astebete de forma paralela la administración pública vasca lleva muchos años trabajando para adoptar sus estructuras organizativas a las nuevas demandas y retos de la sociedad vasca

sailburu nos ha hablado aquí de cómo se está trabajando para avanzar hacia una administración pública más ágil cercana a la ciudadanía y en definitiva una administración pública más avanzada de hecho el plan estratégico de gobernanza e innovación pública pgi dos mil veinte recoge lo citada entre

por la transformación digital ante este escenario le quiero hoy preguntar sailburu por las acciones que está desarrollando su departamento para que la gestión
de las bolsas de trabajo se realice de forma más avanzada eficaz y eficiente eta besterik gabe aldez aurretik eskerrik asko eskerrik asko

herritarrentzat eta baita ere administrazioarentzat berarentzat efectivamente a partir del lunes de la semana que viene el diecisiete de junio las

existentes en las áreas de la administración general seguridad y justicia

pondrá en conocimiento que a partir del uno de julio se pondrá en marcha

un sistema que descansará sobre un portal web que permitirá efectivamente gestionar absolutamente todos los trámites que son necesarios realizar en el marco de las bolsas de trabajo

electrónicos quiero destacar el hecho de que la nueva herramienta que hemos implementado para que esto sea posible se ha desarrollado íntegramente con medios propios es fruto de un trabajo de colaboración entre diferentes entes del sector público autonómico han colaborado entre otros además de función pública el ivap

izenpe y este nuevo sistema va a suponer un salto cualitativo importantísimo en la gestión de las bolsas de trabajo con beneficios tanto para la propia administración como para las personas que integran esas bolsas de trabajo por lo que respecta a la administración

un ahorro de medios personales materiales e incluso temporales importantísimo porque es muchísimo el tiempo que las personas que se ocupan de la gestión de los puestos de trabajo de las bolsas de trabajo llevan a cabo a través de la comunicación telefónica pero también para las personas integrantes de las bolsas de trabajo va a suponer un salto importantísimo

lugar y a través de cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión con internet durante las veinticuatro horas del día y durante los trescientos sesenta y cinco días del año

a partir del uno de julio va a ser posible que estas personas por ejemplo puedan actualizar sus datos de contacto modificar sus preferencias para la búsqueda de empleo

simular situaciones en bolsas de trabajo en relación a los diferentes factores que existen todo esto se ampliará a partir de los siguientes meses antes de final de año de manera que todos absolutamente todos los trámites se puedan llevar a cabo a través de la vía electrónica

y me gustaría destacar el hecho de que hoy por hoy comienza siendo solamente

llegar a ser un auténtico portal del empleo público a través del cual se gestionen no solamente las bolsas de trabajo sino prácticamente todos los procedimientos tanto de selección todas las ope

avanzamos por tanto en la digitalización cumplimos el plan estratégico de gobernanza e innovación pública y

señor otero los objetivos de la futura ley de cambio climático de euskadi se encuentran claramente expresados en el borrador del anteproyecto que está abierto

y a la aportación de cualquier persona desde el pasado día cuatro de junio en la página web del gobierno vasco qué opinión tengo sobre las metas y objetivos que se plantean en el texto de esta ley pues mi opinión no puede ser más favorable y ello no solo porque

que también sino porque propone un objetivo tan ambicioso como lograr

y no solo eso también establece la estrategia y los planes concretos para alcanzar

la meta marcada involucrando a todas las instituciones al sector privado y al conjunto de la ciudadanía y fijando los medios y los recursos necesarios

no es una opción y usted no lo tenía tan difícil señor arriola le bastaba con copiar en febrero su partido en madrid presentó el anteproyecto de ley de cambio climático

pero no este gobierno ha presentado un anteproyecto con objetivos menores sin previsión económica sin objetivos a medio y largo plazo sin reducción

eso sí mucha retórica de cero carbono usted se fue hace dos años a bruselas a anunciar un compromiso de reducción de gases del treinta por ciento para el año dos mil treinta y ahora nos presenta el mismo objetivo para el año dos mil treinta así que de saque

los objetivos que marcó hace poco según su texto el calentamiento global es un problema pero euskadi está haciendo las cosas bien las palabras del gobierno dicen eso pero la realidad no yo le digo señor arriola no es conveniente hacer política climática mirando el titular del día siguiente que es lo que se ha hecho y presentar aquí un texto inmaduro porque usted

o puede usted aparecer con el lehendakari en los congresos que quiera para explicar lo bien que lo hacemos

pero la realidad es tozuda y el titular es otro europa

euskadi un seis coma dos por ciento eso nos pone en la cola de europa en la vanguardia y le digo más porque su proyecto habla de transparencia es muy sintomático que mientras podemos comparar los datos de emisiones de toda europa de dos mil dieciocho

estamos a mediados de dos mil diecinueve y el último inventario nos habla de dos mil dieciséis y no es que no existan datos están en el eustat y se puede observar que en dos mil diecisiete no es que redujéramos poco no es que emitimos

y este señor arriola es el peor dato en quince años un millón de toneladas más que el año anterior para un total

millónes por primera vez desde dos mil doce un retroceso de cinco años cuando el tiempo se está agotando esto no es noticia señor arriola de esto no va a hablarnos usted si los planes y las políticas climáticas nos han llevado a malos resultados es que el diseño y si basamos la ley en los planes y políticas actuales el fracaso está garantizado y termino hablando de responsabilidad en este contexto de emergencia climática señor arriola quien más emite más

y la comunidad autónoma con una media de emisiones superior a europa con una renta superior a europa no se puede esconder nuestros objetivos deben estar por encima de los europeos si queremos ser vanguardia europea la ley debe partir de aquí ustedes saben de nuestro compromiso con este tema solo pedimos una cosa más principio de realidad
y menos alardes de realidad inexistente eskerrik asko otero jauna arriola

zurea da hitza señor otero una cosa son los objetivos previstos en la estrategia de cambio climático dos mil cincuenta

y otra cosa son los objetivos de la ley de cambio climático la estrategia de cambio climático dos mil cincuenta se revisa cada cinco años y lógicamente

a los objetivos que se contemplen en la ley de cambio climático que se apruebe por este parlamento lo cierto es que la lucha contra el cambio climático y de reducir las emisiones de

de la unión europea y deben serlo también del país vasco aun siendo conscientes de que somos una parte minúscula del problema mundial

en primer lugar con la ley pretendemos impulsar un desarrollo económico y social sostenible y neutro en carbono se lo he dicho

del cambio climático en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero mientras en la unión europea

respecto a los niveles de mil novecientos noventa y el gobierno central

nuestro objetivo global es en esta fecha lograr una euskadi

como la que producimos ese es el objetivo que se contempla en el anteproyecto de ley y con esta ley también se persigue la transición hacia un modelo energético sostenible impulsando la eficacia energética

de fuentes renovables pero será el departamento competente en materia de energía

y las actuaciones necesarias para su consecución y es que la lucha contra el cambio climático no va de postureo de ponernos muy estupendos con metas de imposible cumplimiento y quedar muy bien en esta tribuna se trata de ser ambiciosos en los objetivos

pero también se trata de ser rigurosos y realistas para saber

se pueden alcanzar y en cuanto al inventario de gases de efecto invernadero que comentaba tengo que decirle señor otero que no tiene los datos completos se equivoca porque en cuanto a los datos de gases de efecto invernadero tengo que decirle que

están a disposición pública desde principios de este año en la web del gobierno vasco

si es que no lo tiene para que acceda a él y pueda comprobarlos

de datos preliminares sobre estimaciones y será en otoño cuando publique los datos definitivos del año dos mil dieciocho como se publicarán también los datos

lehendakari jauna considera que las directrices presentadas por su gobierno para los presupuestos del dos mil veinte responden a los retos económicos sociales
y ecológicos a los que tiene que hacer frente euskadi los próximos años eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

noski ere nota batzuekin en primer lugar echamos de menos una brecha que no deja de crecer en euskadi la brecha territorial

movilidad oportunidades laborales y también calidad de vida y bienestar

para la lucha contra el cambio climático ya no vale solo

hay que destinarlos a políticas que inicien una transformación profunda del modelo productivo con valentía y con altura de miras y en este terreno señor lehendakari su gobierno es terriblemente conservador y al anteproyecto de ley

es decepcionante y queda muy lejos de lo que euskadi se merece y de lo que euskadi necesita

las directrices presupuestarias incluyen también acertadamente veo que nos han escuchado después de tres meses referencias a las incertidumbres económicas y al riesgo de desaceleración sin embargo solo lo hace desde la perspectiva de los indicadores económicos

sobre esta cuestión lehendakari le vuelvo a preguntar de qué manera el proyecto de presupuestos va a ofrecer protección a personas impresas ante riesgos macroeconómicos

a través de la creación de empleo porque si ese empleo es precario ni habrá seguridad

por si va a encontrar trabajo sino por cuánto le va a durar el contrato ea bere soldata bizitzeko emango duen eta zein

bukatuko eta azkenik por último permíteme que exprese mis dudas

respuesta a los retos de las directrices que dicen que van a responder porque viendo los presupuestos de años anteriores no esperamos grandes cambios

de cuestiones de impacto como el cambio climático mientras tanto escucharé con atención la pregunta

hasta qué punto está usted dispuesto a comprar la estabilidad de su gobierno a cambio de una reforma
fiscal que favorezca a los ricos eskerrik asko martínez jauna denbora agortu zaizu

compromisos de estabilidad presupuestaria y contienen los mimbres para tejer un acuerdo que dé respuesta a los retos presentes y futuros de nuestra sociedad las directrices son una puerta abierta a la negociación con todos los grupos a la negociación con todos los grupos coincidimos en los retos económicos sociales y ecológicos a los que hemos añadido los retos demográficos y de igualdad vamos a afrontar como país la transición tecnológico digital

y la transición demográfico social los presupuestos dos mil veinte son un instrumento fundamental para afrontar con más garantías estos cambios

comenzando por los retos económicos y de empleo contemplamos un nuevo impulso al programa marco de empleo y reactivación económica también a los planes que configuran nuestra estrategia

en términos de cohesión y de justicia social se destinan más recursos a salud educación y políticas sociales reitero

tres de cada cuatro euros priorizan un estado de bienestar centrado en las personas tres de cada cuatro euros defendemos un presupuesto eminentemente social vamos a dar respuesta al resto ecológico y medioambiental

la economía circular infraestructuras hidráulicas lucha contra el cambio climático defensa de la biodiversidad y agricultura ecológica además

con perspectiva de género que priorizan la lucha contra la violencia hacia las mujeres la reducción de la brecha salarial y el fomento de la conciliación laboral y familiar vamos a primar también

impulsando más empleo de mayor calidad y acceso a una vivienda digna que facilite un horizonte de estabilidad y emancipación a la juventud reitero en nuestro ofrecimiento las puertas

y nuestra determinación para alcanzar un acuerdo presupuestario es firme hoy me alegra que usted reconozca que hay ámbitos de acuerdo incluso en la presentación de las directrices económico presupuestarias

consejera con la banca hemos topado este es un viejo tópico de una referencia literaria pero que creo que es muy actual porque

y es también la realidad en la que viven no estamos haciendo una crítica a la banca como instrumento de economía y como instrumento social porque

sí estamos perplejos por la persistencia de esa banca que en parte es la autora de la crisis económica es también en parte muy significativa la autora de la pérdida de empleos de la pérdida de negocios de la pérdida

que ha llevado a que muchos ciudadanos y ciudadanas hayan tenido que sufrir para poder devolver sus créditos hipotecarios y que se han visto envueltos en una situación de impagos involuntarios sobre los cuales la banca ha sido

ha sido antisocial y lo sigue siendo estamos de acuerdo en que por esa función social que tiene y por esos servicios que presta en la economía y en la función social tiene derecho a cobrar por sus servicios pero lo que no tiene derecho es a querer cobrar por sus no servicios cuando un ciudadano no puede pagar su crédito

para reclamárselo es una gestión que tiene que entrar dentro de sus costes que no puede ser imputada al ciudadano y menos cuando se hace de una manera tan abusiva

deudoras en los prestamos hipotecarios en los que por ese servicio de reclamación a veces se pretende cobrar

es el coste de esa actuación por lo tanto el instituto kontsumobide

los usuarios de los servicios del país vasco tiene mucho que decir y además tiene mucho que acompañar

otros poderes que también se han posicionado de manera muy contundente muy claramente el poder judicial hay cientos miles de sentencias que ya establecen que es una situación absolutamente abusiva que afecta a miles y miles de personas

y por eso el poder político también tiene que acompañar el poder público también tiene que acompañar a ese poder judicial sabemos que el instituto

un trabajo en este sentido en defensa de los consumidores y los usuarios que ese trabajo es fundamental para acompañarles en sus reclamaciones y para evitar que se sigan produciendo estos atropellos

domésticas por lo tanto la pregunta tiene un interés público tiene un interés social tiene un interés divulgativo porque en la contestación también se puede albergar referencia para esos ciudadanos y ciudadanas que siguen sufriendo padeciendo esta situación

tienen todo el derecho a resolverlo hoy y a tener a su lado no solamente al poder judicial sino también al poder político de ahí viene la pregunta cuáles son las acciones que está llevando el instituto que está en su departamento en defensa de esos usuarios y consumidores y bueno qué

de seguimiento puede dar a los ciudadanos para que se puedan defender ante

de las entidades financieras con mayor implantación en nuestra comunidad autónoma durante el desarrollo de esas campañas detectamos cláusulas que desde kontsumobide consideramos abusivas

se requirieron contratos de prestamos hipotecarios a las once principales entidades radicadas en euskadi y diez habían incluido esta cláusula entre las condiciones de sus contratos

precisamente el hecho de que este sector el de las entidades financieras uno de los que más preocupación suscita a la ciudadanía hace que realicemos un trabajo de control constante así en los cinco primeros meses del ejercicio dos mil diecinueve hemos atendido ciento cincuenta y ocho solicitudes quinientos sesenta y ocho reclamaciones

esto ha llevado a la incoación de cinco expedientes a empresas del sector bancario

hemos sumado una nueva campaña específica dirigida de nuevo a detectar cláusulas abusivas

han sido estos sus resultados por un lado las actuaciones se han desarrollado en las mismas entidades financieras en las que se actuó en la última campaña salvo una

la distribución de las entidades bancarias por territorio ha sido la siguiente en álava se han inspeccionado los contratos de tres entidades en bizkaia de cuatro y en gipuzkoa también de tres entidades

siete siguen incorporando entre las condiciones de sus contratos la cláusula abusiva de comisión por posiciones deudoras en prestamo hipotecario dos de las entidades

iniciado además una propuesta de sanción por no colaboración las conclusiones provisionales señalan nueve incumplimientos y sus propuestas de expedientes sancionadores si estos prosperan ascienden a un importe total de quinientos ochenta mil euros por tanto

y utilizaremos todos los mecanismos que concede la ley para evitar estas conductas abusivas y lesivas de los derechos de las personas consumidoras muchísimas gracias eskerrik asko

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

es verdad había un compromiso ya hace dos años de que este año había que darle una vuelta hicimos una reforma fiscal

ahora anuncia otra y yo tengo mucho interés en saber cuál es la línea que va a seguir la reforma fiscal que usted anuncia eskerrik asko alonso jauna

yo no he anunciado ninguna reforma fiscal yo no he anunciado ninguna reforma fiscal entre otras cosas porque esta es una competencia que corresponde a las juntas generales de los tres territorios históricos

hace una semana lo que afirmé fue lo siguiente hace tres años acordamos la reforma fiscal

así lo haremos y nuestro compromiso es evaluar para mejorar siempre desde el acuerdo eskerrik asko

ya me imaginaba que iba a venir usted caminando sobre las aguas como siempre pero claro

mediante un acuerdo y nadie sabe en qué consiste pero es verdad que

que ha puesto un gobierno en esta cámara que usted preside

de poca comunicación pero alguna relación tendrán y gobiernan también las tres diputaciones vascas donde tienen un socio que ahora les permite una mayoría para abordar esa reforma

y usted no puede permanecer ajeno a la realidad y usted no puede encapsularse aquí yo no tengo nada que ver con lo que ocurre a mi alrededor yo no tengo nada que ver con las decisiones que toman los partidos

nadie lo entiende así solo lo entiende usted así todos los demás lo entienden de otra manera entraba hoy aquí y me preguntaban a ver cómo de cabreado estaba yo esta mañana

no porque ustedes no intenten que efectivamente estemos muy cabreados

y siempre es así ese es el contexto político que crea el contexto político

con usted que está en sabin etxea

que gobierna en las instituciones principales del país vasco y yo creo que

entonces usted tiene que favorecer un contexto pero hay un problema de fondo que ese es el problema que a mí me preocupa y el problema es quién es usted y quién es el partido nacionalista vasco

usted no nos dice cuál es la reforma fiscal si van a subir los impuestos si se van a bajar pues depende de con qué socio porque a ustedes les da igual lo que emiten permanentemente es que son incapaces de convertirse en una fuerza transformadora de la sociedad y que lo que son

acaparadora del poder y lo demás da igual este año por lo visto había una sensación de que querían ustedes acordar con nosotros

yo la sensación que tengo es que este año querían negociar con nosotros porque la negociación del año pasado les salió mal con bildu

y si negociaran con el pp será bajar impuestos y si tienen mayoría en las diputaciones con el partido socialista qué va a ser

que yo podría compartir la política presupuestaria sin compartir la política fiscal porque yo he venido aquí a hacer política y a compartir políticas serias

los vascos que más le importan son los vascos que están afiliados al partido nacionalista vasco y nada más tiene usted que definir qué política quiere yo no estoy dispuesto a apoyar gobiernos yo he estado siempre dispuesto a apoyar políticas pero lo que no se puede convertir es este parlamento en un mercadillo hoy le ofrece a podemos mañana a bildu

me eleva a una categoría señor alonso en fin yo no sé si está usted cabreado o no

la función que tenemos cada uno en el seno del partido nacionalista vasco lo sabe de sobra a pesar de que en los medios de comunicación o en la opinión pública esto se siga distorsionando

creo que no está muy centrado hoy en la intervención porque me ha hablado de muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es la reforma fiscal que yo no he anunciado en cuanto a la reforma fiscal cuando corresponda el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi supongo

en relación a los criterios que también acordamos con ustedes el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi con ustedes con el partido popular en la reforma fiscal

para la reforma fiscal que entró en vigor el uno de enero del año dos mil diecisiete y que fueron dos los criterios contribuir a generar actividad económica y favorecer la creación de empleo y garantizar la estabilidad y la sostenibilidad de los servicios esenciales para la ciudadanía estos son los criterios que pactaron el pnv el partido socialista y el partido popular

se han superado los niveles de recaudación del año anterior y ha mejorado la lucha contra el fraude fiscal beraz egonkortasuna balio positibo bat izan da

asumimos el compromiso de evaluar los resultados con la experiencia de tres ejercicios por lo tanto con el horizonte dos mil veinte tal y como firmaron también ustedes los resultados de la reforma fiscal acordada insisto que están siendo positivos la actividad económica ha crecido estos tres años y se han generado nuevas oportunidades de empleo un dato en enero del año dos mil diecisiete había novecientos dieciséis mil personas inscritas en la seguridad social

mire yo defiendo la conveniencia de armonizar la fiscalidad en los tres territorios históricos y en este sentido le recuerdo tanto que ha hablado usted de mercadeo de abrir la puerta o de pactar con unos y con otros le recuerdo que ustedes

en las juntas generales de araba con eh bildu el partido popular con eh bildu eh bildu con el partido popular

una desarmonización fiscal en todo caso la reforma fiscal acordada en el año dos mil diecisiete insisto que se ha demostrado eficaz el acuerdo comprometía la realización de una evaluación de resultados tras tres años de

y junto a las diputaciones forales realizaremos la evaluación y tomaremos en consideración los nuevos elementos que se han puesto de manifiesto
estos últimos años en cuando al gobierno vasco va a seguir centrado en lo que el sistema fiscal actual vigente permite hacer eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

uno de los cuales al igual que ella tiene consideración de víctima de violencia por parte de su aita sentencia firme

a salir de casa encontrando lugar seguro en casa de una amiga de forma temporal el agresor en un acto más de violencia le da de baja del padrón

y desde entonces y hasta ahora maría con sentencia firme y orden de alejamiento ya caducada porque ha pasado mucho tiempo

un ingreso indispensable para la cobertura de las necesidades básicas y las de sus hijos

como maría hay cientos de mujeres en euskadi supervivientes de violencias machistas supervivientes al patriarcado y supervivientes a unas instituciones que no siempre

dicen los movimientos sociales de lucha contra la exclusión que lanbide ampara la violencia machista que emakunde no les cunde y que la pobreza mata pero lanbide es quien las remata

tienen un claro sesgo patriarcal y eso tiene un impacto directo en la vida de muchas mujeres y sus familias

que ilustra por qué nos preguntamos y le preguntamos qué está haciendo emakunde para que el sistema de garantía de ingresos asegure el ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres

el sistema de garantía de ingresos que es un sistema que ampara el ejercicio de un derecho ciudadano es al mismo tiempo un sistema que trata a las mujeres como si fueran responsables únicas de su situación de pobreza hay cientos de mujeres que como maría ven cortada su prestación todos los meses por una clara falta de perspectiva de género en la atención en los criterios y en las normas que aplica lanbide

tenemos que encontrar el camino para que el sistema de garantía de ingresos proteja a maría y a tantas otras mujeres necesitamos que emakunde actué y ponga a lanbide las gafas moradas

les va la vida en ello decenas de resoluciones del ararteko que se acumulan año a año que lanbide rechaza o no responde y mientras tanto la señora artolazabal con el piloto automático y mientras tanto al menos en nuestra impresión emakunde agacha la cabeza y hace como que esto no va con ella

una que no tiene perspectiva de género y que va a precarizar aún más estas situaciones una reforma que emakunde ni siquiera conocía

una reforma que quieren ustedes dirigir para tapar las vergüenzas de una pésima gestión de su gobierno y que no terminan de solucionar bloqueada por ser profundamente antisocial pero sobre todo porque dicen que quieren hablar pero no se mueven y como yo al menos hay una parte de lo que usted me va a responder que ya se me me adelanto algo que usted ya sabe y es que en euskadi hablamos de euskadi pero que el hecho de que haya iniciativas para ampliar derechos en el conjunto de la ciudadanía del estado no le da a usted carta blanca para recortar derechos de la ciudadanía vasca

señala los principales objetivos de intervención del gobierno vasco y del resto de niveles administrativos la autonomía económica de las mujeres es una cuestión prioritaria y en esta línea emakunde junto con lehendakaritza coordina el plan estratégico contra la brecha salarial en el que están involucrados

el objetivo es garantizar la autonomía económica de las mujeres de forma que no tengan que hacer uso que no tengan que hacer uso de la renta de garantía de ingresos u otros sistemas de apoyo y en los casos en los que no sea posible alcanzar esa autonomía económica

a la renta de garantía de ingresos ayudas de emergencia social y pensión complementaria de vivienda ha contribuido a la estabilidad económica con una significativa reducción de los indicadores de pobreza estructural como bien sabe señora guanche

en estricto cumplimiento de la ley y su correspondiente normativa reguladora aprobada en esta misma cámara con un amplio consenso de los grupos parlamentarios

lehendakari jauna eskerrik asko cuidado con los discursos ambivalentes que no tengan que hacer uso de los sistemas de apoyo

algo de lo que nadie debería avergonzarse y algo de lo que el máximo exponente de este gobierno no debería tener pena

utilizar y ejercer sigo pensando que queda trabajo por hacer

porque le he dicho que el objetivo es garantizar la autonomía económica de las mujeres de forma que no tengan que hacer uso garantizar la autonomía

uso de la renta de garantía de ingresos u otros sistemas de apoyo y le he dicho también que en los casos en los que no sea posible alcanzar esa autonomía económica

ha contribuido y seguirá contribuyendo a la estabilidad económica en todo caso ha hecho referencia usted también a la ley

y el gobierno considera que la ley puede ser mejorada evidentemente y por ello los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno presentaron una proposición de ley que un año después un año después hoy

y no es por falta de voluntad del gobierno no

para actualizar y mejorar el sistema de renta de garantía de ingresos debemos incorporar la perspectiva de género interseccional en las políticas sociales señora guanche así por ejemplo se ha tomado en consideración de manera especial a las familias monoparentales con mujeres a cargo de las mismas mire sinceramente

el gobierno esperamos que en breve se inicie la tramitación de la propuesta por parte de este parlamento y que los grupos que han solicitado posponer

el debate en esta cámara esperamos que los grupos aprovechen la oportunidad para hacer sus aportaciones y entre tanto no tenga duda de que el gobierno va a seguir comprometido con la igualdad y la protección social de todas las personas evitando cualquier tipo de discriminación eskerrik asko

señor lehendakari la decisión del dos mil doce se le atribuyo a quien la tomó y a quien votó a favor entre otras a su partido que

votó a favor y defendió que con esa decisión de privatizar la red de fibra óptica y las acciones no se ponían en riesgo el arraigo de euskaltel zegona no tiene mayoría ya lo sé pero zegona manda

en euskaltel por qué la señora consejera de su gobierno dice que les hemos pedido por favor que no entren a cuchillo no es que manden dueños y señores de euskaltel solo a quien es dueño y señor de algo se le pide por favor que no entre a cuchillo porque saben que efectivamente

comprar reparar y vender ustedes también deberían pasar por tres fases han pasado por dos ojalá lleguen a la tercera la primera ha sido negar la realidad negaron la realidad y todavía tienen atisbos de seguir negando la realidad cuando ponen en cuestión el control de zegona negaron que se fuera a perder el arraigo

fuera de euskal herria y en intereses ajenos a euskal herria luego una segunda fase es la de justificación es decir no es tan malo el plan

cuenta con el apoyo de todos los accionistas cien por ciento de apoyo entonces no será tan malo

pasen ustedes a una tercera fase después de negar la realidad y después de justificar la realidad pasen

para recuperar el control de euskaltel y eso pasa por una toma de un paquete significativo de acciones por parte del gobierno vasco de forma directa por el impulso para que kutxabank haga lo propio

del beneficio a costa de todo lo demás en euskaltel siga adelante los directivos

no vamos a derramar lágrimas por ellos son la guardia pretoriana de erauzkin son la gente que nos han traído hasta aquí

que han invocado al diablo y en cuando el diablo ha aparecido lo primero que ha hecho ha sido zampárselos

la ejecución pública de la directiva de euskaltel lo que significa es que zegona no va a reparar absolutamente en nada

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor casanova se lo dijo la consejera señora tapia

la desconfianza permanente y en la opción de la negativa siempre mire euskaltel es un proyecto considerado estratégico su arraigo es una ventaja competitiva y se ha protegido

lo demuestra el acuerdo de accionistas en el año dos mil quince reitero

cualquier cambio en los elementos de arraigo de euskaltel sede social fiscal centros de trabajo marca red y dirección efectiva

superior al setenta y cinco por ciento del capital el gobierno vasco ha mantenido sí en todo momento la relación con euskaltel y también con los nuevos representantes de zegona y la compañía ha aprobado

en su consejo de administración por parte de todos los accionistas un nuevo plan estratégico centrado en la competitividad de la empresa las sinergias internas y la expansión en el mercado de las telecomunicaciones plan estratégico aprobado por unanimidad de todos los accionistas la relación se va a mantener

para que euskaltel siga en la vanguardia tecnológica y sea tractora de la digitalización de euskadi y todo ello con el objetivo de generar más riqueza y por lo tanto

que se pueden aplicar en formas de anticipos avales créditos reintegrables e incluso con la opción de toma de participación en proyectos estratégicos son muchos los casos en los que hemos podido contribuir a la continuidad de la actividad y el empleo tubos reunidos es el ejemplo de esta misma semana beraz casanova jauna ez izan zalantzarik eusko jaurlaritzak eta erakunde publikoek

felicitando a la empresa másmóvil la quinta empresa vasca en capitalización bursátil

señor lehendakari es la segunda vez que le pregunto en cuatro meses sobre esta cuestión las razones del retraso de la regulación en materia de violencia de género le pregunté en febrero sobre esta cuestión y queremos saber exactamente las razones que están llevando a este retraso esta regulación estaba prevista en el calendario en el programa legislativo

dos mil dieciocho y por lo tanto llevamos seis meses de retraso y señor

una referencia al estado de la tramitación de la cuestión en concreto porque ya nos la sabemos sabemos que el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho se dio inicio al procedimiento de elaboración

anteproyecto de ley sabemos la resolución del consejo de emakunde para que se abra a información pública

pero como le decía esperemos tener buenas noticias y sobre todo que nos aclare las razones del retraso en una materia prioritaria y que teníamos ya que tener

esta regulación en el parlamento vasco para su tramitación parlamentaria eskerrik asko

señora garrido nuestro criterio es favorecer a través de esta propuesta normativa un gran pacto de país un gran pacto de país por la igualdad y contra la violencia machista hacia las mujeres

que la nueva ley se vinculara a la actual ley de igualdad y esto llevó su tiempo

con la ley de igualdad vigente ha elaborado un primer anteproyecto de ley de modificación de la ley de igualdad y de erradicación de violencia machista contra las mujeres este anteproyecto se presentó como usted ha dicho en el consejo de dirección de emakunde

que en dicho consejo de dirección de emakunde celebrado el seis de marzo todos los grupos parlamentarios tienen representación también el grupo popular

de lo que es el proceso de tramitación de esta iniciativa legislativa considerada como gran pacto de país el consejo con representación de todos los grupos el suyo por lo tanto aprobó abrir un periodo de audiencia e información pública esta es la razón y este es el tiempo en el que estamos eskerrik asko

yo lehendakari le tenemos que agradecer su esfuerzo pactista ya hemos visto y el presidente de mi partido

arre que so parece ser el partido nacionalista vasco en cualquier caso

de la nueva regulación en materia de violencia de género señor lehendakari tres años de legislatura esto simplemente es una muestra de la inacción de este gobierno esta es la tónica de su gobierno hace dos

creo que fueron muchos los portavoces parlamentarios los que le reprocharon

de producción legislativa en relación a los compromisos adquiridos en el calendario legislativo veintiocho proyectos de ley señor lehendakari cinco aprobados de esos otros tres

a un año de la celebración de las elecciones autonómicas que es cuando toca no sabemos si serán antes y digo que es la tónica general porque luego le vuelvo a preguntar a una consejera de su gobierno a la señora artolazabal también

que ha culminado el plazo comprometido para remitirlo al parlamento vasco y no tenemos noticias del mismo que es la modificación de la ley para la infancia y la adolescencia

de cuatro meses una nueva pregunta pero ha tenido que ser así por lo tanto entenderá el reproche que es absolutamente lógico y desde luego

información deliberaciones concretas y todo eso está muy bien pero ustedes tuvieron un compromiso ustedes

cuando el plazo que ustedes mismos se pusieron para remitir

en el consejo de gobierno era antes de finalizar el año dos mil dieciocho por lo tanto lehendakari creo

falta de diligencia en esta materia ya le digo que es una muestra más pero es la tónica general de su gobierno esperamos que

legislatura podamos ver este proyecto de ley y esperemos que no sea

señora garrido no voy a entrar en los que es la falta de diligencia sobre esto

señora garrido de la misma manera que yo entiendo que usted haga reproches entiendo también que sería bueno que atendiera a lo que yo respondo y que además plasmara

usted ha manifestado en esta tribuna en su turno de intervención

en relación a lo que es la iniciativa legislativa de la que estamos hablando hemos considerado que este sí es un gran pacto de país el necesario y como tal ha necesitado de convenir que iniciativa legislativa nueva expresamente para la erradicación de la lucha de la violencia o contra la violencia contra las mujeres o bien era una vinculación con la ley de igualdad existente esto ha llevado

le he hecho referencia también a lo que es el consejo de dirección de emakunde donde usted está representada mire la ley es un instrumento estratégico

la participación se han organizado sesiones abiertas en los tres territorios

se han llevado a cabo presentaciones en comisiones o a comisiones grupos y colectivos implicados se ha prestado apoyo a las asociaciones de mujeres para facilitar las aportaciones

para ampliar el plazo de las alegaciones el resultado es que hemos recibido trescientos aportaciones de la sociedad civil y más de un centenar de distintas administraciones beraz

emakunde está trabajando dando cumpliendo a todos los requisitos legales exigidos y en este momento contamos con el segundo borrador de la ley que pasará por las comisiones de coordinación

así como la comisión de seguimiento del segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas se están solicitando los informes preceptivos requeridos en el proceso de elaboración

se remitirá también al consejo económico social al consejo de relaciones laborales y a la junta asesora de contratación además de a la oficina de control económico y la comisión jurídica asesora con sus aportaciones se elaborará el documento definitivo y los presentaremos antes de que finalice el año

gracias señora presidenta buenos días a todos señor lehendakari consejeros señora consejera hasta esta última promoción

de internado permaneciendo de lunes a viernes en la academia

de seguridad este régimen ha cambiado y a partir de ahora es decir a los integrantes de la promoción veintiocho van a tener que ir a diario a la academia y solo se les pagará la comida

o bien alquilar un piso en las inmediaciones más afrontar los gastos de desayuno y de cena y se supone que estos gastos tendrían que afrontarlos con el sueldo que reciben de la academia pero recordemos que este sueldo no llega a los seiscientos euros y que se gastaría prácticamente en la pernocta en la manutención o en los viajes en algunos casos incluso pudiera

suficiente y por eso vemos cómo algunos de los aspirantes han dicho que tendrán que utilizar sus ahorros pero qué va a suceder con aquellos que no los tengan

a la formación y esto que pudiera parecer anecdótico sin embargo es importante de cara a

que las setecientos plazas de la ope de su departamento no se han cubierto nos podría

ha sido finalmente el número de los afectados pero no deja de llamar la atención que siendo el trabajo en la administración una oferta atractiva siendo la ertzaintza una institución reconocida por la sociedad vasca por primera vez no se hayan cubierto todas las plazas disponibles

y por eso insistimos que llama la atención que entre esas cuatro mil trescientos cincuenta personas no se hayan podido encontrar setecientos aspirantes válidos quizás debemos preguntarnos si nos puede aclarar usted hoy aquí

y por qué como digo no se han conseguido esos setecientos aspirantes válidos cree usted señora consejera

toda la ope se debe a que la ertzaintza ha perdido atractivo

eso así no cree que la modificación del régimen de pernocta incrementará esta falta de atractivo qué medidas va a tomar su departamento al respecto y por último en qué va a consistir

óptima de las necesidades formativas de los servicios de seguridad pública de euskadi y la primera necesidad tiene que ver con la reposición de las bajas por jubilación que se están produciendo en la ertzaintza

que también se están incrementando las ofertas de policías locales de plazas de policía local en los distintos ayuntamientos y también los servicios de prevención y extinción de incendios de hecho mañana mismo están llamados a examinarse en el bec de barakaldo

para cubrir doscientos setenta plazas de treinta y seis municipios doscientos setenta plazas de policías locales

que entrarán a formar parte de esos cursos formativos de la academia de arkaute baina berriro ere ertzaintzaren beharretara nator

y desde luego no hace falta que le recuerde por qué el porqué de esa media los recursos del gobierno español que no

por eso ahora nos vemos en la necesidad de convocar promociones más numerosas

plazas así lo hemos hecho también en esta promoción veintiocho que

de cerrar las listas definitivas se ha ampliado a seiscientos sesenta y cinco no es la primera vez en la historia de la ertzaintza que en una promoción no se cubre

con convocatorias menos numerosas el alojamiento de la academia era una opción que se les ofrecía a los y las alumnas cada persona elegía libremente si se alojaba en la academia o bien acudía diariamente desde su domicilio en adelante es cierto contarán con el régimen de comida gratuita de alojamiento en cualquier caso tengo que decirle que los cursos el plan de formación no se basa no está basado para nada en el programa de internado eskerrik asko

señora consejera es verdad que ha habido otras promociones en las que no se completaron pero lo que no ha dicho es que en esos años en los que no se completaron

a la ertzaintza y quizás eso también tenía algo que ver pero también lo que le he dicho

se va reduciendo el número de aspirantes por eso le digo si ello no le preocupa y si precisamente estos cambios no van a afectar a la falta de atractivo

la falta de espacio se debe a que las habitaciones se han convertido en clases para la formación de otras policías o miembros de otros

del espacio necesario y mejorar las condiciones y por eso le pregunto dado que ese espacio ya no hay cómo van a sufragar el transporte se han planteado subir el sueldo como la demanden en el consejo de la ertzaintza algunos sindicatos

los sindicatos los que resuelvan el problema de transporte a la academia porque no me ha contestado ese sistema que usted ha anunciado en qué va a consistir porque creo que es importante creo que es importante y que realmente cambiar el sistema de formación el poder pernoctar en la ertzaintza va afectar a futuras promociones ya sabía que me iba a sacar

ningún impedimento por qué no han cubierto las setecientos plazas no cree que con las medidas que han tomado no las van a cubrir eskerrik asko

mire señora llanos nos preocupa que la selección sea adecuada es decir que se selecciona a las mejores personas para ejercer esta profesión y que la formación sea adecuada la mejor formación pero conceptos como formación e instrucción no se deben mezclar con la logística de alojamiento

al igual que ocurre en otros centros de formación de otras policías en las

han podido decidir en cada uno de los momentos orain hori da desagertzen den gauza bakarra gainerakoan

va a haber en la academia más de mil aspirantes a la policía vasca recibiendo formación por tanto y es verdad tienen que organizar sus desplazamientos

también la academia está en ello ya les ha facilitado una vía de contacto para la gestión de sus necesidades de movilidad y al mismo tiempo desde el departamento estamos trabajando

es decir en este aspecto tampoco hay desatención por parte de la
academia ni por parte del departamento eskerrik asko eskerrik asko

xehetasun hori ere aipatu behar da de todas maneras sí es cierto que existiendo un problema laboral hay que atajarlo y hay que poner todos los medios para ello quizá

osalan estaba intermediando no es la palabra se había solicitado su colaboración para mejorar el proceso y para que atendiera en aspectos técnicos todo aquello que se pudiera llevar adelante

disponible de tal manera que las denuncias que se habían presentado fueran atendidas se solicitó la asistencia técnica de osalan para mejorar si fuera necesario para que de alguna forma actuara dando sus consejos para mejorar la situación

nos han comentado que se han constituido las correspondientes comisiones para analizar los casos que se habían presentado estas comisiones han trabajado con total independencia y desde luego confidencialidad como no podía ser de otra manera y se espera en breve que emitan una resolución además

toda normalidad asumiendo las funciones que les corresponden y tal y como usted señalaba en el próximo consejo de administración se está buscando el consenso

para asumir dos aspectos relevantes por una parte el nombramiento de un nuevo

el que exista un nuevo organigrama para el funcionamiento del conjunto de la actividad

eskutik ziurgabetasunaren aro ilunenean sartu gara foessa presentaba recientemente un informe que ya es ilustrativo de la realidad desde la primera línea

habla de un empleo que combina bajos salarios parcialidad indeseada y temporalidad y que provoca entradas y salidas recurrentes al empleo y de cómo la intermitencia y la precariedad nos están conduciendo a un escenario en el que trabajar ya no garantiza nada no supone un escudo

casi la mitad de las familias un cuarenta y cinco coma tres de las familias en las que hay un empleo

lo que evidencia una calidad en empleo insuficiente para cubrir las necesidades de los hogares

y si la tasa de desempleo se sitúa por debajo de un diez por ciento es verdad

las tasas de exclusión se disparan en el caso de las personas con jornadas parciales y en el caso de las que tienen jornadas temporales y el contrato indefinido tampoco se libra porque también el nueve por ciento de las personas con contrato indefinido están también en una zona de exclusión evidentemente las mayores tasas de pobreza y exclusión

que están en situación de desempleo eta horregatik da larria eta gordina eta krudela

consiga las competencias contempladas en el estatuto de autonomía en materia de políticas pasivas de empleo el empleo está considerado como un pilar social y junto con la educación y la salud constituye la estructura básica de nuestro modelo de sociedad

su calidad la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo la reducción de las situaciones de desempleo y la debida protección de las personas que sufren esa situación las políticas de empleo se clasifican en dos categorías las políticas activas y las políticas pasivas

se consideran las políticas activas aquellas orientadas a que encuentren trabajo las personas desempleadas es decir facilitar su inserción en el mercado laboral

no se le puede atribuir la solución de los desajustes del mercado de trabajo este mercado es subsidiario de la política económica y la marcha de esta es la que condiciona sus principales resultados sin embargo el papel de lanbide como instrumento de activación laboral es su mejor contribución a la vertebración social del mercado de trabajo

a euskadi sus funciones se basan en la intermediación laboral mediante un modelo basado en la activación mediante la corresponsabilidad y el empleo es nuestra prioridad el empleo es el eje básico de nuestra actuación como gobierno

reducir las tasas de paro por debajo del diez por ciento y lo estamos consiguiendo para ello incentivamos políticas públicas de carácter económico y social que tienen como objeto

a la creación de más empleo y de más calidad la gestión de estas políticas requería

tanto las políticas específicas de empleo como las políticas que inciden en el desarrollo económico el empleo y la reactivación económica por tanto están indisolublemente unidos

las que proporcionan a las personas desempleadas una remuneración sustitutiva del empleo es decir las prestaciones y los subsidios por desempleo el gobierno vasco tiene marcada entre otras como trasferencia prioritaria la gestión de las políticas pasivas de empleo

han sido ignorados por el estado que como usted dice continúan invadiendo y pisoteando repetidamente las competencias relacionadas con las políticas de empleo nosotros vemos ahora otra oportunidad de materializar esas competencias pendientes de ser trasferidas y ahora también usted ve esa oportunidad en el nuevo gobierno del estado para conseguir esa trasferencia

es prioritaria porque nos permitiría hacer una política de intervención ante posibles situaciones de exclusión pero de manera integral

en una interpelación que usted me hacía al principio de la legislatura coincidíamos que gracias al sistema de garantía de ingresos euskadi soportó mejor el impacto de la crisis económica así pudimos ofrecer a la ciudadanía que agotaba el subsidio por el desempleo unos recursos

que evitaran su caída en la exclusión pero no podemos confundir las políticas pasivas de empleo que tienen por objetivo el mantenimiento de rentas de quienes no tienen empleo con las políticas asistenciales que también son parte de las políticas sociales la transferencia de las políticas pasivas por tanto se encuentra dentro de las prioridades fijadas por el acuerdo de coalición y en el programa de gobierno además de contar con el respaldo mayoritario de esta cámara

así se lo hemos hecho llegar al gobierno central a través de los diferentes interlocutores y los diferentes foros y en la ficha trece del informe sobre actualización

se contempla la solicitud de la gestión del sistema de protección social por desempleo esa gestión incluye las prestaciones específicas por desempleo tanto en su nivel contributivo

de análoga naturaleza no se trata por tanto de una nueva cuestión ya que

lleva realizando durante esta legislatura y los gobiernos anteriores también

señora kortajarena lo que sí quisiera trasladarle es que nosotros seguimos trabajando

y además consideramos importantes los acuerdos de amplio consenso que se han ido dando en esta cámara instando al gobierno de españa

por lo tanto el único camino a recorrer en esta cuestión

que la administración del estado se sume a ello dicha implicación traerá consigo acuerdos políticos eficaces que redundarán en beneficio de la ciudadanía vasca

transferentziatzat hartzen dira por tanto como le decía señora kortajarena el gobierno vasco asume la labor de negociación desde una

realista ofreciendo en la comisión mixta un calendario de transferencias que permite organizar

en ese calendario de transferencias las políticas pasivas de empleo se contemplan como una transferencia prioritaria mila esker

me parece haber entendido que evidentemente no le da igual entiendo que no le da igual pero eso no quita que para que aquí siga habiendo algo que va mal y tenemos una una disfunción muy clara que pasa por tener un impulso muy importante de las políticas de empleo políticas que sean verdaderamente eficaces

unas medidas que había tomado macron y decía frantziako gobernuak

le he trasladado señora kortajarena en mi primera intervención cuál era el marco de actuación del que disponemos como gobierno somos conscientes de que no es un mensaje novedoso sabemos que llevamos décadas reclamando las transferencias no realizadas y contempladas en el estatuto de gernika pero considero que el momento actual es distinto

y todo ello hace que miremos con optimismo los futuros pasos que se puedan dar

porque el traspaso de estas políticas posibilitará el despliegue de una política de empleo global y una atención de lanbide con mayores dosis de eficiencia pero es clave diferenciar en esta cuestión

son universalistas generalistas y están dirigidas a toda la población mientras que las políticas asistenciales están dirigidas a personas en situación de emergencia social

esta diferencia es muy importante para saber cuál es el título habilitante para ejercer competencias y legislar en uno u otro terreno la renta de garantía de ingresos

la situación de desprotección de las personas y su límite debe entenderse en esa frontera

euskadi demuestra que lo que gestionamos directamente funciona mejor

en el año dos mil trece al nueve coma noventa y siete en el año dos mil dieciocho

menos de larga duración en euskadi crece la afiliación de la seguridad social con ochocientos setenta y dos mil seiscientos personas en el año dos mil trece y en dos mil dieciocho

van bien pueden ir mejor y para ello estamos todos implicados para conseguir mayores logros y mayores objetivos pero la colaboración interinstitucional

está dando sus frutos en esta carrera de continuidad por eso es importante que el estado cumpla y transfiera lo pactado y previsto en el estatuto de gernika

como usted decía dos recursos de inconstitucionalidad que tienen como base la inversión competencial que realiza el estado en materia de políticas activas de empleo

considera el estado que concede la denominación de subsidios elemento que se debe tratar como política pasiva a programas que suponen acompañamiento a las personas desempleadas para que estas retornen al mercado laboral

el objeto de las ayudas económicas se enmarcaría en el ámbito de las políticas activas de empleo que es competencia del gobierno por tanto su tramitación y gestión le correspondería a lanbide

de este modo como le indicaba aplicaríamos y gestionaríamos desde una perspectiva global las necesidades de las personas desempleadas

con aquellos en las que no las tenemos y la reclamación al estado de la gestión de las políticas pasivas de empleo y sus convenios es el octavo compromiso de nuestro programa de gobierno

en el congreso en la cámara vasca y en los diversos foros políticos en los que participamos y ustedes se suman ahora esa reclamación y eso es algo positivo nosotros

en la comisión mixta de transferencias seguiremos velando porque el estado no

y seguiremos reclamando el traspaso de las políticas pasivas de empleo mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

de este gobierno plasmados en el programa legislativo aprobado para esta legislatura y tenemos hoy

del pésimo balance de la producción legislativa de este gobierno el gobierno también tenía previsto el gobierno vasco tenía previsto

la presente legislatura la aprobación en el consejo de gobierno del proyecto de ley de modificación de la ley para la infancia y la adolescencia

noticias ninguna noticia en relación a esta modificación por lo tanto también queremos saber

en la aprobación del proyecto de ley correspondiente eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea señora garrido este gobierno está trabajando por el cumplimiento de sus compromisos la elaboración de esta ley por la que usted me pregunta está estrechamente condicionada por la aprobación por parte del estado de la ley orgánica de protección

de la legislación que garantice la protección integral de los niños contra la violencia y asegure su aplicación a todos los niveles a la vista de la citada recomendación la administración general del estado inició en el segundo trimestre del pasado año dos mil dieciocho el anteproyecto de ley orgánica de protección integral

y con ello lo que se pretendía era establecer una regulación estatal más completa ante las situaciones de violencia hacia los niños y las niñas y también los adolescentes ese contenido de esa ley es de carácter básico y por tanto de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas de las comunidades autónomas

porque la ley española condiciona por su carácter básico la ley que podemos nosotros tramitar desde nuestra responsabilidad como gobierno vasco se produce

criterio de prudencia nos vimos obligados a retrasar el inicio de los trabajos en la elaboración del borrador del anteproyecto de ley porque era preciso conocer el avance del procedimiento de tramitación y elaboración del mencionado anteproyecto

se exige como garantizar la concordancia de la normativa autonómica con la normativa estatal y evitar que el texto de la modificación incluyese disposiciones o normativas tuvieran que contravenir lo dispuesto en la normativa básica

de lo que sí que es competencia nuestra por tanto el retraso se ha debido a que en el gobierno

no ha sido posible dada la inestabilidad que se ha dado la aprobación de esta ley que tiene carácter básico y que por tanto nosotros ante

hemos iniciado la tramitación de la ley vasca para intentar cumplir

con un pequeño retraso la aprobación de dicha ley a finales de año eskerrik asko artolazabal andrea

sí señora consejera incapacidad del gobierno del estado que ustedes han apoyado en dos versiones antes

mariano rajoy apoyando los presupuestos de los gobiernos del partido popular y luego cambiando haciendo un viraje y apoyando el gobierno o

al señor rajoy y apoyar en consecuencia un gobierno del señor sánchez apoyado por todo una serie

ustedes ahora la razón es la falta de regulación del estado

de las cortes generales de una materia esencial en otras ocasiones no esperan tanto

estatales y en otras ocasiones no solo no esperan tanto a las regulaciones estatales si no

y no les importa que los conflictos correspondientes

en este caso el tribunal constitucional por lo tanto señora consejera entenderá que me suena un poco a excusa y si no permítame que le diga le tengo que decir que entonces este gobierno que ha incumplido sus propios compromisos y ya le digo que esto no es una cuestión aislada esta parlamentaria y este grupo parlamentario hoy ha planteado dos cuestiones a este gobierno sobre dos retrasos en dos regulaciones

de gobierno la primera ha sido la regulación de la materia de violencia de género pero es que es la segunda vez que le pregunto a este gobierno y en concreto en esta cuestión al lehendakari sobre este materia es que el proyecto de ley

estaba prevista antes de finalizar el ejercicio dos mil dieciocho le pregunté al lehendakari sobre esta cuestión en febrero le he vuelto a preguntar hoy y en el mejor de los casos ha dicho que se remitirá esa regulación

un proyecto de ley de modificación de la ley para la adolescencia y para la infancia

el plazo que ya ha pasado el plazo comprometido en el calendario legislativo por lo tanto le tengo que decir que ya no es un gobierno que no cumple que es evidente que no cumple

señora consejera hasta la fecha cinco aprobados otros tres porque tenemos ocho leyes aprobadas pero esas tres no venían en el programa

la incapacidad absoluta de este gobierno en aprobar normativa esencial

en materia de producción legislativa y en lo que a su departamento se refiere también un suspenso y un cero bastante grande eskerrik asko

argumentos que le he trasladado no son ninguna escusa usted sabe lo que cuesta tramitar una ley en este gobierno

contar con la ley básica que el estado estaba trabajando en el cual esta comunidad autónoma ha trabajado de una forma intensa para que pudiéramos ahorrarnos

que si nosotros iniciábamos su tramitación éramos conscientes que en algún momento deberíamos actualizar por tanto ese era el objetivo más

hemos priorizado la definición y la generación del desarrollo normativo y durante este tiempo hemos ido avanzando en cosas que sí que tienen que estar reflejadas en esa ley futura que va a venir a modificar la ley de infancia del año dos mil cinco ese nuevo texto legal lo que tiene que tener es un enfoque multidisciplinar e integral y tener en el centro de nuestras políticas y acciones

nuestro compromiso era haber traído este proyecto de ley en el primer cuatrimestre y esperemos que en diciembre del año dos mil diecinueve

más importante del sistema fiscal vasco es fraude fiscal decía

y es que la importancia del asunto que nos trae a esta interpelación entre otras cuestiones en las negativas consecuencias económicas en la reducción

del objetivo de la fiscalidad que es el de la redistribución de renta y de la riqueza sabe usted perfectamente señor azpiazu que el fraude fiscal

antisocial de personas de empresarios y de empresas que no quieren pagar lo que deben a las haciendas públicas es por ello que reducir el fraude es imprescindible para poder hacer frente a las necesidades financieras del sector público vasco que además es un tema de interés para la ciudadanía vasca porque mientras unos defraudan a manos llenas la gran mayoría paga

señor azpiazu no puede hacer la ingeniería fiscal que está en manos de una minoría zubiri eta bere taldeak egin zuten iruzur fiskalari buruzko

diez euros son recuperados para la administración

indarrean administrazio horiek es imprescindible seguir adoptando medidas y atender a los agujeros del sistema que facilitan que algunas personas

lo tengan fácil para no contribuir justamente con el pago de unos impuestos con los que se pagan finalmente los servicios públicos de toda la ciudadanía vasca

pero voy aún más allá y voy a los números hemos visto que en los últimos ejercicios pasa algo que realmente nos preocupa a elkarrekin podemos que los ingresos han aumentado

es decir cada vez se pagan menos impuestos y esto no pasa porque sean los y las trabajadoras quienes pagamos menos

y voy a dar solo algunos datos que demuestran esta tendencia y

de ley de presupuestos que al final no se aprobó por este parlamento el primero

tenemos por un lado cómo lo aportado por rendimientos de trabajo incrementa en un dos coma uno por ciento respecto a dos mil dieciocho y sin embargo vemos cómo lo aportado por ganancias patrimoniales se reduce un veinticuatro coma uno por ciento como resultado total qué nos encontramos

a costa de los y las trabajadoras de euskadi en segundo lugar impuesto de sociedades lo recaudado por ganancias patrimoniales una vez más se reduce un veinticuatro coma uno por ciento y la cota diferencial neta se reduce un uno coma siete por ciento en definitiva por impuesto de sociedades

un tres coma siete menos que en dos mil dieciocho en total unos cincuenta millónes de euros

y ya lo predijo zubiri cuando pactaron ustedes la rebaja fiscal con el partido popular que se les estaba regalando a los empresarios entre setenta y cinco y cincuenta

incrementa un cinco coma seis por ciento respecto a dos mil dieciocho y en total son doscientos veintitrés millónes de euros más

es simple que los y las trabajadoras pagan más mientras que el capital paga menos por una parte

que los y las consumidoras pagamos más mientras los empresarios pagan menos y es así le guste o no no sé si compartirá o no lo que digo pero bueno nuestro sistema fiscal no permite que euskadi tenga unos ingresos justos porque al final siempre somos las personas de a pie

negros que tenemos por un lado los regalos que desde el partido nacionalista vasco partido socialista y partido popular

no sé si se acuerda usted cuando en dos mil diecisiete decía que había margen para subir la presión fiscal en el impuesto de sociedades pues ya le digo que de dos mil dieciocho a dos mil diecinueve se prevé que decrezca el mismo un tres coma siete por ciento

al señor rementeria que ya ha escuchado que el señor alonso quiere volver a la senda de los regalos por navidad y por otro lado

la sanidad o las políticas sociales porque hay algunos sinvergüenzas que directamente no pagan lo que tienen que pagar si pagan algo

y repito todo lo que esté en su mano para obligar a esas personas a que cumplan con su deber como ciudadanos y ciudadanas en ese sentido desde elkarrekin podemos hemos incidido y seguiremos incidiendo en dos direcciones que me gustaría que usted y su gobierno compartieran la primera

y en segundo lugar en dotar de mayor autonomía y democratización a la comisión de lucha contra el fraude fiscal más que nada para que dicha comisión sea un instrumento eficiente con todo su potencial posible ya que creemos que en la actualidad no está siendo así es indudable que hay margen para avanzar señor azpiazu

hay posibilidades normativas hay recursos económicos y hay recursos humanos para mejorar pero lo que vemos que falta es la voluntad política entonces

esa voluntad política para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal eskerrik asko

y la de su grupo respecto al tema del fraude fiscal inquietud que comparto al cien por ciento

al fraude fiscal no se le puede dar ninguna tregua y hay que trabajar desde todas las instituciones para erradicar el fraude fiscal completamente de acuerdo

usted ha apelado de todas formas y le quiero hacer como un previo

que lo conozco perfectamente que tampoco pone tan mal el fraude

y es verdad que los macroeconómicos nos dan unas cifras globales que intentan aproximarse a cómo es la realidad pero luego la realidad de fraude no se conoce precisamente porque es fraude

la labor que hacen las instituciones fundamentalmente las diputaciones

es una tarea complicada es una tarea que tienen que seguir haciendo con

que lo hacen de esta manera digo que usted está interesado en esta cuestión porque ha realizado varias solicitudes de información acerca de las evaluaciones de los planes

y si los datos no me fallan su grupo tiene registrada también una proposición

sobre la composición y funciones de la comisión de lucha contra el fraude fiscal como usted sabe la normalización de una estrategia colaborativa contra el fraude fiscal

vasca del año ochenta y nueve hacía sobre el fenómeno del fraude fiscal y su trascendencia y de las actuaciones que las diputaciones forales venían realizando hasta el momento

en el país en otoño de dos mil trece cuando el parlamento vasco aprobó varias resoluciones sobre el particular y más en concreto cuando se creó

la comisión de lucha contra el fraude fiscal del país vasco

de los pasados ejercicios y a petición singular de los grupos parlamentarios representantes

de la comisión que he mencionado han comparecido en esta sede al objeto de dar cuenta de los planes aprobados y a su hilo de los resultados detallados obtenidos

en relación al recientemente aprobado plan conjunto del año dos mil diecinueve

de septiembre en este contexto su interpelación resulta particularmente oportuna en el tiempo ya que

acaba de concluirse y espero que será remitido a este parlamento e incorporado a las páginas web correspondientes

para la necesaria transparencia y publicidad que para este tipo de cuestiones resulta conveniente y necesaria de estos antecedentes y como una primera conclusión para poder dar respuesta a su interpelación solo puedo opinar y deducir que

a la lucha contra el fraude fiscal en euskadi las instituciones vascas competentes en la materia esto es el gobierno y las diputaciones forales cuentan con una estrategia coherente conjunta y bien estructurada que se está siguiendo y cuyos resultados

día a día aunque como he dicho el último informe disponible se hará público de manera inminente no me resisto a sin desvelar

del mismo por lo demás bastante exhaustivo resumir

su estructura sus novedades y unos pequeños comentarios finales

valoración del ejercicio dieciocho ha de apuntarse que se registra gran actividad de intercambio

aumenta el volumen de datos obtenidos por las haciendas forales a partir de las distintas fuentes de información habilitadas lo que facilita la detención de incongruencias de los datos declarados por los contribuyente y la realización

de las actuaciones de regularización y cobro especialmente destacable que durante el año dieciocho ha comenzado a normalizarse la recepción

con trascendencia tributaria de origen internacional obtenida en el marco de los acuerdos y compromisos en este ámbito promovidos especialmente desde la comisión europea

tipo de acciones en que se estructura el plan conjunto las acciones preventivas son medidas de naturaleza diversa que tratan de dificultar la comisión de fraude y minorar

incluyen desde controles de acceso a determinadas situaciones de riesgo fiscal hasta actuaciones de promoción de buenas prácticas tributarias y concienciación y educación

dentro del plan de lucha contra el fraude porque su correcta implantación permitirá evitar la realización de actuaciones fraudulentas de los obligados tributarios adelantándonos a su comisión se trata de un tipo de acciones más difíciles de evaluar muchas de ellas no tienen un resultado inmediato pero son fundamentales para reducir de forma estructural la al fraude y tienen un efecto directo en las actuaciones

si se previene el fraude si no se comete sería innecesaria la dedicación de recursos para realizar actuaciones de regularización y de cobro el plan

volvió a destacar los dos principales proyectos de programación plurianual incluidos en esta área de acciones preventivas del fraude fiscal el proyecto de educación tributaria que usted conoce perfectamente y el proyecto ticket bai

en el área de acciones de regularización y cobro es decir aquellas encaminadas a la comprobación e investigación o verificación y en su caso regularización de la situación fiscal de los obligados tributarios por los órganos de gestión e inspección así como aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos de recaudación para obtener el pago de la deuda la cifra de la deuda descubierta

del nivel de actividad de los servicios que participan en la lucha contra el fraude fiscal y además puede estar afectada por la orientación

que adoptándose en el ejercicio concreto pueden que no se agoten sus efectos en el mismo año o incluso que ni siquiera tengan incidencia en él sino que

por ello tiene mayor significación una lectura de los resultados con una perspectiva temporal más amplia que las estrictamente anual no obstante como se verá y como podrá usted comprobar señor bollain a través de la publicación de los resultados

del plan dos mil dieciocho en lo detectado irregularizable resultan

eskerrik asko azpiazu jauna la verdad que creía que iba a ponerse medallas pero

que tampoco lo haya hecho porque es que de verdad

del informe de la comisión que entrará dentro de poco en el parlamento y me ha leído los mismo tres ejes que ya me suenan porque son los mismos ejes que se traían anteriormente

año a año y realmente creo que si miramos la perspectiva temporal si miramos los números realmente creo que nos demuestra que queda mucho por hacer y lo que es

por eso si miramos la evolución de la recaudación de cuotas dejadas de ingresar porque no digo todo lo recaudado por fraude ya que aquí también se incluyen otros aspectos y otros conceptos derivados de recargos o de multas solamente

en dos mil diecisiete a quinientos noventa y uno millónes de euros en dos mil dieciséis a setecientos cuarenta y nueve millónes de euros en dos mil quince y a setecientos sesenta y dos millónes de euros

pues porque vemos cómo una recaudación recuperada de setecientos sesenta y dos millónes en dos mil catorce el primer año que tenemos estos resultados en la comisión de lucha contra el fraude fiscal

en dos mil quince cayó en trece millónes de euros la recaudación de dos mil quince a dos mil dieciséis cayó

mientras que la recaudación recuperada en dos mil diecisiete no alcanza los niveles de dos mil catorce y se mantiene sesenta y siete millónes de euros por debajo y

no llega ni a un treinta por ciento de lo defraudado solo a las administraciones de euskadi y creemos que hay margen de mejora señor azpiazu y que hay mucho margen de mejora

anuales de fraude estimado en los estudios citados anteriormente

porque no creo que pille por sorpresa a nadie una parte importante de lo recaudado si vemos los informes se centra en relación al fraude del impuesto de sociedades

eta zergatik ez diogu lanari ekiten en opinión de los expertos señor azpiazu una lucha realmente eficaz contra el fraude fiscal puede conllevar un descenso de la tasa de economía sumergida hasta situarse por debajo del diez por ciento

por debajo del diez por ciento no es una cifra baladí sino que es la tasa de economía sumergida que tienen aproximadamente los países más avanzados en esta materia de lucha contra el fraude fiscal y decía usted que no estamos tan mal pero sabes cuál es esta cifra en euskadi es del diecisiete coma cuatro por ciento

la presión fiscal usted es euskadi a las personas más ricas nosotros planteábamos en este mismo parlamento

una propuesta de reforma fiscal sin embargo ustedes pactaron pues las rebajas fiscales con el partido popular

y un incremento de ingresos anual inferior al incremento de la economía vasca para que todos y todas lo entendamos mientras en dos mil diecisiete

los ingresos suponían un trece coma ocho por ciento del pib en dos mil veinte se prevé que estos ingresos solo supongan el trece coma tres por ciento

esto que implica que en dos mil veinte vamos a recaudar aproximadamente cuatrocientos millónes de euros menos de lo que recaudaríamos sin este pacto entre derechas en el que el partido socialista fue un simple convidado de piedra pero volviendo a la propuesta de reforma fiscal que presentó elkarrekin podemos

era la lucha contra el fraude fiscal y proponíamos medidas que en un primer paso pudieran recuperar unos quinientos millónes de euros más de lo que se hace en la actualidad

en la actualidad pues que igualaríamos las cifras de economía sumergida de los países más avanzados

y como le decía antes no hemos avanzado nada o me atrevería a decir que incluso hemos retrocedido

en gastos fiscales muchos de los cuales se utilizan para eludir impuestos de forma injusta aunque legalizada por ustedes sin embargo uno de los grandes agujeros negros del sistema fiscal de euskadi es este y ustedes siguen pasándolo por alto

nosotras hemos presentado propuestas para acabar con esta lacra usted mismo ha dicho que tenemos alguna iniciativa pendiente y yo creo que está en su mano que nos sentemos y que podamos profundizar en este camino porque hasta ahora creemos sinceramente que
desgraciadamente no se ha hecho lo suficiente eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

señor bollain podríamos hablar de fiscalidad pero yo creo que hoy vamos a hablar de fraude fiscal que era la pregunta que usted me ha realizado

medallas el fraude fiscal hay que abordarlo siempre con humildad yo creo que es un tema que

todos tenemos que luchar contra el fraude y todos tenemos que seguir trabajando para cumplir el objetivo de llegar al diez por ciento que dice usted incluso menos pero seguramente nos va a costar porque no es fácil

es una tarea que yo creo que los países lo abordan con bastante seriedad en muchos casos y también les cuesta un esfuerzo con lo cual yo creo que hay que dar un margen

para que efectivamente con la colaboración de todos vayamos peleando contra esa lacra que es

reiterativo tan reiterativo como el cúmulo de iniciativas que a lo largo de las últimas legislaturas

y la lucha emprendida contra esa cuestión lo cual es de valorar lo cual es de valorar tengo la convicción personal que la actitud de las haciendas forales y el conglomerado público respecto al tema que nos ocupa

para concluir esta segunda parte de mi respuesta a su interpelación le daré solo un pequeño

en la conciencia de las administraciones tributarias vascas de todas el dato es que las haciendas forales y ello es comprobable están incrementando los efectivos

y en particular lo que también aporta un mensaje social claro y nítido en relación a la importancia que las administraciones tributarias vascas dan a la lucha contra

y se refiere a la importancia que damos a la cifra del fraude descubiertas realmente no es un tema cuantitativo no es una cuestión de importe de hecho lo ideal es que el fraude descubierto

fuera cero después de hacer todos los esfuerzos por supuesto

plenamente concienciada respecto a las obligaciones tributarias de todos pero eso no pasa en ningún caso ni en ningún país del mundo y sin embargo debemos luchar para que eso pase

como el propio gobierno vasco por último y por contestarle a su pregunta de manera directa estimo que

respecto al fraude fiscal los resultados son satisfactorios están bien orientados dan resultados y transmiten la seriedad debida en los sectores a los que se dirigen y le digo el resultado que conocerá dentro de poco es mejor de los que usted ha comentado en esta

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta consejeras consejeros señorías señora murga
buenos días en relación con esta interpelación

mucho la atención que por segundo año consecutivo las oficinas de farmacia quedaban excluidas de la orden de catorce de mayo de dos mil diecinueve

la consejera de comercio consumo y turismo que era una orden importante

de apoyo a la modernización a la inversión de los establecimientos comerciales vuelvo a decir una orden que había tenido su

todos estos años y que curiosamente algo ha pasado en estos dos últimos años las farmacias las oficinas de farmacia excluidas de las órdenes

del gobierno a la modernización de establecimientos comerciales que es algo como lógico las oficinas además de establecimientos comerciales efectivamente

de interés público al servicio de los ciudadanos pero efectivamente gozan de esas dos características

de eficacia de eficiencia como todos podemos comprobar

pero sobre todo su colaboración y su puesta a disposición de la ciudadanía permanentemente además tenemos que decir y tenemos que observar y es una cuestión

las importantes inversiones que las oficinas de farmacia en relación con la modernización la informatización no hablemos de estos últimos años

proceso de implantación de la receta electrónica en muchos casos

en las oficinas de farmacia de comercialización hemos visto cómo esas importantes inversiones se han puesto

lo que decía antes de la receta electrónica que luego se implantó

inversiones y desarrollos informáticos y tecnológicos que ahí están y efectivamente es una cosa muy llamativa el hecho de que en una orden de la consejera de turismo comercio y consumo

ese programa de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales

no serán beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden las actividades económicas

que se refieren a venta al por mayor o alguna venta más específica como la de los coches u otros que tienen unas características muy especiales pero

farmacias comercio al por menor de medicamentos productos sanitarios

es decir que esta cuestión quede al margen de lo que es una actividad comercial al uso

quede al margen de la preocupación del gobierno vasco por implementar actuaciones por mejorar actuaciones en su actividad comercial

además de la esencialmente sanitaria que también pero son dos actividades esenciales que realizan un mismo negocio una farmacia pues es ciertamente llamativo me podría decir que la interpelación

y que igual tenía que haberla hecho a la consejera

lo que pasa después pero yo sí que quiero conocer su valoración

de salud como jefa de los servicios sanitarios de este país y en relación con si ustedes han podido hacer algo si han hecho algo por qué el

no se sale el gobierno vasco de lo que ha sido además una actitud habitual durante otros años y este y el año pasado

centro comercial o como establecimiento comercial las farmacias pues su profesionalidad

sus horarios su obligación de cara a los ciudadanos

comercial que además les hace merecedores de una atención seguramente especial

y a mucha gente le llama la atención sobre todo en estos años

de qué elementos son los que se invierten en los que no se pueden invertir en reformas o en electrónica o en

la propia orden desarrolla y que les afectan a muchos comercios

y las farmacias no pues no lo entendemos o sea que siendo un establecimiento de interés

además un ejemplo de colaboración público privada en relación con sus funciones tenemos llamar su atención y decirnos qué opina usted de esta exclusión

esta orden de la consejera de comercio del gobierno vasco el documento de airef

sobre la mesa parece que van a desgastar un poco

del gobierno vasco tenemos que decir además como un elemento que refuerza

la calidad la competencia y las posibilidades de las oficinas de farmacia

además está mejor que la media española españa dispone de la red de farmacias comunitarias más

de francia y de alemania o sea que es un factor para entender que esta discriminación que hacen ustedes en relación con la orden

más increíble siendo españa un ejemplo de cómo se desarrollan las oficinas en ese sentido el país vasco mejor porque además colegiados de farmacia es decir la profesionalidad de los establecimientos comerciales a través de colegiados farmacéuticos si en españa la media es del dos coma cuatro

por establecimiento en el país vasco la mayor cifra de españa es de tres coma tres

o sea que en ese sentido además de cumplir los requisitos de una manera esencial importante competente eficiente

son excluidos de las ayudas del gobierno vasco no lo entendemos señora consejera sabemos que no es su estricta responsabilidad pero usted puede decir algo aquí desde luego

algún otro debate pero en cualquier caso sí que queremos conocer esa valoración en relación por qué esta discriminación
inexplicable a las oficinas de farmacia a través de las disposiciones de gobierno vasco eskerrik asko barrio jauna erantzuteko murga anderea zurea da hitza

señor barrio como sabe me interpela acerca de una orden de ayudas de la consejera de salud de turismo comercio y consumo perdón en concreto sobre la orden de catorce de mayo de dos mil diecinueve de la consejera de turismo comercio y consumo por la que se regula y convoca para el ejercicio dos mil diecinueve

a la modernización de establecimientos comerciales una orden que se aprobó en consejo de gobierno y que cuenta con el aval del gobierno vasco

responde al plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte en el que se identifican las áreas prioritarias

sobre la base del programa de gobierno para la duodécimo segunda legislatura en concreto responde en el ámbito del comercio interior al eje establecido para la modernización y rejuvenecimiento del sector el objetivo de este eje

y percepción social del comercio prestigiarlo profesionalmente

y acompañar su modernización para ello se impulsan programas que promueven la inversión en renovación

modernización de los establecimientos comerciales con criterios

y coherencia estratégica con el mencionado plan es por tanto en este contexto donde debemos ubicar la orden de ayudas por la que me interpela

estas órdenes o programas de ayudas suelen incorporar una serie de modificaciones y adaptaciones con el paso del tiempo

de las circunstancias necesidades y prioridades de cada momento para así introducir criterios de eficiencia en el destino de los recursos

en este caso las modificaciones que planteó el propio departamento de turismo comercio y consumo

de priorizar al comercio de proximidad de nuestros barrios pueblos y ciudades y a los sectores que más apoyo de lo público necesitan

defiendo de manera firme las farmacias la gran labor que realizan el valor que aportan al sistema sanitario y la contribución que realizan a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas usted conoce bien

que tenemos con las farmacias en el marco del actual modelo de farmacia asentado en el papel de la farmacia comunitaria

son un agente más del sistema de salud en coordinación con el resto de niveles asistenciales y con los servicios sociales pero las farmacias responden a otras circunstancias diferentes al comercio de proximidad

en la orden de ayudas del departamento de turismo comercio y consumo además como he dicho dicha orden de ayudas ha sufrido algunas modificaciones importantes en concreto en el dos mil dieciocho

al emprendimiento comercial este programa de ayudas permite la incorporación de nuevos agentes al sector comercial vasco y posibilita un rejuveneciendo del sector y la incorporación de nuevos modelos a un escenario de cambio disruptivo para dotar a este programa que ha sido muy demandado históricamente por el sector se efectuó

de programas maduros como es el caso del programa de modernización de establecimientos comerciales esta reordenación tuvo previamente

comercio y consumo en el caso del programa de modernización de establecimientos comerciales la orden de ayudas no había sido actualizada desde hacía

por lo tanto una reflexión y como consecuencia una optimización de recursos que es la responsabilidad del gobierno como gestores de estos recursos

de modernización de establecimientos comerciales hay por tanto una necesidad de reasignación y priorización de los recursos públicos de modo se destinen a aquellos sectores comerciales que cuentan con más dificultades objetivas para su modernización o incluso para su mera supervivencia

el departamento de turismo comercio y consumo se ha buscado en definitiva el bien común la ayuda al eslabón más débil del sector comercial

mejor puede ayudar a la otra función que tiene que es la creación de redes de apoyo ciudadano y la articulación de nuestras calles pueblos y barrios

y por lo tanto eximen también de estas ayudas a los comercios situados en polígonos industriales o en zonas de extrarradio asimismo son excluidos

como comercio tradicional y como decía el departamento de turismo comercio y consumo ha estimado necesario

una priorización de las ayudas públicas para que estas sean otorgadas a quienes más lo necesitan decisión que respeto profundamente

de lo público además no podemos olvidar que las farmacias son un sector regulado un área de actividad económica en la que convive el ejercicio de la actividad de libre mercado

esto hace que las farmacias partan de unas circunstancias diferentes diferentes respecto a otros sectores del comercio que operan

como he dicho previamente el sector farmacéutico es un sector fundamental para el departamento de salud y por ende también para el gobierno vasco y contará siempre con nuestro apoyo este apoyo se traduce por ejemplo

fruto de la colaboración entre el gobierno vasco y los colegios oficiales de farmacia y oficinas de farmacia

convenio para el tratamiento con opiáceos de personas dependientes de los mismos a través de las oficinas de farmacia el convenio para la prevención del vih y otras enfermedades de transmisión sexual el convenio para la mejora del uso de la medicación en personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliara o el programa de seguimiento

a pacientes crónicos y polimedicados asimismo me gustaría señalar que el departamento de salud tiene establecida una compensación económica anual en el caso de las farmacias vec que son aquellas que por su ubicación en zonas con poca población

además a esto hay que añadir que en el año dos mil diez

de farmacéuticos del país vasco recibió una subvención directa de dos millónes de euros para la implantación de la receta electrónica en el conjunto de las farmacias vascas

todos ellos son programas importantes que se llevan a cabo en estrecha colaboración entre las oficinas de farmacia el departamento de salud y osakidetza colaboración que seguiremos manteniendo
que somos plenamente conscientes de la importante función que estas entidades cumplen eskerrik asko eskerrik asko murga

explicar una cuestión que no compartimos con ustedes es decir no nos ha dado

claras y contundentes de por qué las farmacias no están están excluidas de una orden en relación con la modernización de los establecimiento comerciales es algo increíble y arbitrario es decir

que hace unos años se tuvo que subvencionar

de la receta electrónica no quiere decir que todo ese sistema que se puso en marcha hay que mantenerlo durante todos estos años mejorarlo perfeccionando como están haciendo ya las farmacias sin su ayuda pero en ese sentido es que es increíble es increíble que esa cuestión de relación íntima entre un establecimiento de productos sanitarios y con la ciudadanía

nunca ha estado más pertinente una moción en este sentido para pedir a este parlamento que reintegre en las próximas órdenes

farmacias al plan a los programas de ayudas del gobierno vasco en relación con la modernización nos ha explicado lo que la consejera de comercio consumo y turismo ha dicho pero no nos ha dicho si está usted conforme o no ya ese que es un tema porque yo creo que

de dar confianza de dar confianza a los establecimientos

de decirles qué garantías van a tener en el futuro cómo les va seguir ayudando el gobierno vasco en su labor también comercial juntamente con la de interés público y el de interés sanitario yo creo que

alguna petición no solamente de este parlamentario sino de algún

de que necesitan un poco más de confianza últimamente están recibiendo bastantes malas noticias del gobierno vasco pero en cualquier caso se excluye la farmacia porque hay que apoyar los comercios de proximidad pero pero qué es la farmacia más que un comercio de proximidad pero igual es el ejemplo de comercio

la panadería me dice el señor prieto pero la farmacia comercio de proximidad pero

la ley de ordenación farmacéutica de euskadi les obliga a estar próximos a la ciudadanía y eso no es un comercio de proximidad es tremendo lo que usted me dice y no es un comercio vamos a ver

los medicamentos que los médicos nos mandan a los pacientes y que vamos a comprar con nuestra receta con nuestra tarjeta

pero qué tiene la farmacia a parte de las cuestiones que tienen que ver con otras cuestiones

segura la alimentación infantil la higiene personal los cuidados del bebe

eso no es un comercio no es un comercio en toda regla eso no hay que protegerlo es que es incomprensible ha sido una decisión arbitraria la de la consejera de comercio consumo y turismo en relación con este tema yo creo que se han equivocado se ha equivocado el gobierno vasco y cuando se equivoca el gobierno vasco lo fundamental es rectificar es rectificar y en ese sentido se lo vamos a pedir se lo vamos a pedir a través de la moción que presentaremos

también hay veces hay que construir argumentos tocaba actualizar la orden

pues quitamos a las farmacias es que no tiene sentido no tiene sentido

la del departamento de comercio consumo y turismo que reasignación priorización de recursos públicos pues eso de eso estamos hablando nosotros bien común pues menos bien común

se resquebraja y desde luego no hemos compartido su valoración sobre esta situación su descripción más que valoración porque la valoración

eso tiene que hacer usted un análisis por esta orden de la exclusión y también por el decreto de residencias que también les afecta ese es otro tema seguiremos hablando
pero desde luego se han equivocado por favor rectifiquen y si lo dice ahora no habrá moción muchas gracias eskerrik asko

barrio jauna en euskadi somos pioneros en el ámbito de la atención farmacéutica

viene colaborando y trabajando conjuntamente con los colegios oficiales de farmacéuticos y con las oficinas de farmacia en el desarrollo de los programas de atención farmacéutica

son muchos años de colaboración fructífera hace ya veinticinco años que comenzamos este camino conjunto y hay que echar la vista atrás y recordar

y de salud en las que vivían determinados colectivos de personas ante las necesidades que les planteamos desde el sistema sanitario y ahí estuvieron las farmacias

de alto nivel y grado de dificultad es de justicia que yo como usted reconozcamos su importante labor pero hoy venimos a hablar

muy concreto el de una orden de ayudas que no es del departamento de salud es cierto que las farmacias realizan también una labor comercial pero no es menos cierto que su situación poco o nada tiene que ver con las pequeñas tiendas de barrio los comercios locales que se ven abocados

y a adaptarse a las nuevas necesidades sociales o desaparecer además

ya ha tenido ocasión de beneficiarse de la orden de ayudas que hoy nos ocupa según me ha trasmitido el propio departamento de turismo comercio y consumo

por la orden de ayudas de modernización de establecimientos comerciales antes de la modificación he solicitado al departamento de la sailburu sonia pérez los datos de la última convocatoria y le puedo decir que una dotación

las farmacias obtuvieron en el dos mil diecisiete más

sinceramente me alegro mucho por supuesto de que esta orden de ayudas haya podido beneficiar a este sector

es estratégico pero como he dicho previamente

ha hecho un análisis de necesidades y si ellos y todos nosotros como gobierno hemos determinado que hay otros colectivos y entidades que necesitan más este tipo de ayudas es una decisión que debe respetarse por nuestra parte seguiremos apoyando

y lo estamos haciendo desde la consideración de que la prestación farmacéutica es un elemento clave para conseguir mayor calidad

egun on guztioi egun on murga andrea cambiar de caras no sirve de nada si no hay un cambio de rumbo en las políticas del ejecutivo

usted no ha cambiado ni de políticas ni de gestión ni de rumbo ni nada de nada

de osakidetza y si actúa igual va a acabar igual

tanto los expedientes informativos abiertos como las conclusiones de los informes internos elaborados traduciendo me dijo

el expediente y las conclusiones que hemos elaborado y no todos los exámenes para que la justicia haga su investigación y saque sus conclusiones ojo cuidado zuekin nola aritu behar garen señora murga utilizando la ironía y el tono jocoso del portavoz del gobierno eso es colaborar con la justicia eta audioa entzunda ere

cómo se puede saber quién accede o no a los exámenes cómo lo sabía usted

sale el audio y una vez más en vez de apoyar defender e ir de la mano de los que denuncian de los que quieren cambiar esas prácticas ese fraudulento proceder lo que hacéis desde el gobierno es cargar contra esas personas de una manera sucia

perdón a todos esos profesionales y a la sociedad vasca

de que reconozcáis el daño causado y ya va siendo hora que

para la no repetición porque tiene tela tiene mucha tela por no calificarlo de otra forma uno

a la que fuera secretaria del ebb es como poner a maroto

en la gürtel de instructor de la gürtel y a la que

y por no comentar y no calificar sus manifestaciones racistas y de obstrucción a la justicia

tiene que ser independiente y neutral políticamente y eso no es compatible

porque lo que va a primar va a ser los intereses del pnv y no conocer la verdad dos no trasladarle a la justicia

considerarla no esencial quién decide qué es esencial o no dicha actuación

qué más estáis ocultando qué más estáis ocultando aparte de no colaborar y obstaculizar

buenos días señora consejera eguerdi on guztioi hace ya

en el transcurso de este año nosotras elkarrekin podemos nos hemos mantenido en lo que dijimos el primer día en las oposiciones de especialistas hospitalarios de osakidetza existen filtraciones para favorecer a unos pocos

negarlo todo por cierto reciclando incluso discurso del difunto azkuna cuando ya tuvo que dar explicaciones por algo similar en este mismo parlamento en mil novecientos noventa y seis algo ha pasado pero estamos siendo transparentes

no se puede concluir nada dijeron ni que haya habido filtraciones ni que no haya habido pero estamos siendo transparentes vamos a hacer que parezca que hacemos

mire creían que todo iba a ser como en aquel entonces como en mil novecientos noventa y seis cuando belén greaves

meteremos la pata pero no la mano deseando que los tribunales resolvieran los fallos que en aquella ope se habían detectado

con las corruptelas y no lo han hecho ayer

a las doce cuarenta veinte minutos antes del segundo examen viene julen

a todos todos para dentro estaba desencajado agobiado

hay muy malas notas tenemos un problema da la sensación de que encima ha habido unas cuantas personas con notas excesivamente y el resto está suspendido a quince minutos la primera reacción del tribunal fue levantarnos querer disolver el tribunal y marcharnos

una de las integrantes del comité evaluador su colega

debacle y encima ha habido tres personas que han salido para arriba empezó a decir los nombres

cuenta esta vocal que en aquel momento de nerviosismo y revuelo del tribunal

yo ese examen ni lo había puesto ni lo había visto se defiende el autor comisionado por el ivap fue su compañero valero hoy imputado alguien de txago tenía que haber sido abunda ballesteros sobre el autor del examen

pero ni si quiera quisieron utilizarla más allá de servir como excusa para hacer repetir la prueba de esta especialidad desde el primer momento hemos denunciado la opacidad

del que han hecho gala diferentes cargos de osakidetza el anterior consejero usted misma y hasta el lehendakari seguimos denunciando esta opacidad este manto que todo lo tapa y que permite que unos pocos puedan conservar su reino de taifas tal y como denunciamos ya

denunciamos en sede parlamentaria que no se le había facilitado a la fiscalía toda la información disponible para que pudiera realizar su trabajo de forma garante y pese a ello emitió un decreto demoledor y la semana pasada supimos que efectivamente

porque no se le había aportado las declaraciones de las personas implicadas ni las actas de las reuniones celebradas por los tribunales y ahora sí

se ha visto obligada a entregar el material completo las trascripciones escritas de las declaraciones que se realizaron por miembros del tribunal y personas opositoras en la investigación interna de osakidetza tras las denuncias de filtraciones no

lo estamos comprobando estos días gracias a la publicación de los audios

el departamento de salud de la mano de sus máximos responsables y el propio lehendakari han defendido en todo momento

sin embargo se entregó a la fiscalía la documentación escrita y editada y no los audios originales unas trascripciones sesgadas por estar incompletas

dado que no se aportan las declaraciones de las personas implicadas ni las actas de las reuniones celebradas por los tribunales

con las declaraciones realizadas y la totalidad de las actas las reuniones que hubieran mantenido los tribunales todo esto viene a corroborar que efectivamente

sino con el ánimo de ocultar y sin embargo siguen manteniendo que se ha investigado con trasparencia y rigor hoy como el primer día mantenemos

han realizado una pésima gestión de la crisis de las ope dopadas con la intención

hemos mantenido en todo momento que un cambio de caras no es suficiente si no hay voluntad clara por parte de sus máximos responsables

un modelo que consiste en favorecer a unos pocos a través de la filtración de exámenes y contrario a garantizar la igualdad de oportunidades que debe regir en el acceso al funcionariado y que muchos de los interrogatorios recogidos en los audios que osakidetza realizó en su investigación interna vienen a corroborar

el martes pasado un miembro de su gobierno indicó que su consejería no remitió en su día toda la documentación porque su volumen es ingente y se envió lo que se consideraba más esencial señora consejera en este pen drive caben cuatro gigabytes que ocupa todo

de la juez instructora no estamos diciendo que se haya destruido ninguna prueba aunque escuchando a su compañero de gobierno se podría pensar que excusatio non petita accusatio manifesta estamos diciendo

la información y cabía en un pen drive cada día

audios como el que se desprende de la investigación de la categoría de cardiología y en el que la instructora

interroga a una vocal del tribunal de cardiología hace casi un año cuando su departamento lo dirigía el señor darpón yo si voy a poner ese audio

ez dago power point eta gauza horiek bueno en otras ocasiones se ha podido hacer creo que usted lo habrá escuchado

no somos jueces y las responsabilidades políticas que pudieran derivarse ya se van a ir viendo pero desde luego lo que el audio contempla son dos cosas

no aprobó con ayuda usted misma se lo dijo y dos que la doctora obieta ha colaborado para acabar con las filtraciones sabiendo ahora que es usted conocedora de la práctica corrupta de las filtraciones de las ope de osakidetza

señora murga tiene intención de colaborar de una forma eficiente con la justicia en el llamado caso

egun on comenzaré mi intervención haciendo una aclaración

haber pronunciado en una conversación informal hace quince años

he pronunciado esa frase ni hace quince años ni ahora nunca he formado parte de ningún tribunal por lo que nunca he participado en la preparación de las pruebas de acceso a osakidetza nunca

ni en las decisiones de los tribunales la única información a la que he tenido acceso en relación a los resultados de las diferentes ope se ha producido

nunca he tenido información adicional nunca he tenido conocimiento de personas que hayan participado en ninguna filtración de ningún examen por lo tanto

nunca pronuncié esa frase no lo hice hace quince años ni ahora creo en la justicia

voy a seguir colaborando para el total esclarecimiento de esta cuestión estoy convencida de que este esclarecimiento completo va a fortalecer el sistema público vasco de salud por y para el que trabajo desde hace más de treinta años nire ahoan

cuando me propusieron dejar mi actividad como médico asistencial hace menos de tres años

a ser consejera de salud lo hice plenamente consciente de que podía estar expuesta a descalificaciones públicas sin fundamento

esta semana se ha hecho realidad he escuchado la grabación en la que se me menciona es una referencia muy breve se puede escuchar a una personas que dice que dije

una frase relacionada con filtraciones en una ope esa afirmación es falsa la persona que realiza esa afirmación

no ofrece ningún dato ningún indicio ninguna prueba

hace quince años en su declaración detalla un encuentro casual conmigo en mallorca en aquel momento yo trabajaba como profesional en osakidetza facultativo especialista de área adjunto

no formaba parte del tribunal examinador no tenía conocimiento alguno más allá de lo que estuviera publicado esta persona pone en mi boca una afirmación que parece recordar a la perfección

no ofrece ningún dato ni prueba ningún hecho concreto sobre ninguna filtración

y no menciona ningún otro nombre lo afirmo alto y claro en sede parlamentaria yo no he dicho esa frase

con toda seguridad porque nunca he tenido ninguna información que me condujera a afirmar algo así lo afirmo porque nunca he tenido ningún conocimiento de esos hechos que menciona no tenía ese conocimiento no lo tengo

no lo dije y no digo esa frase señora ubera

ustedes están haciendo un uso inapropiado y malintencionado de una frase que se me atribuye y que no he dicho ustedes

sí mientras se celebra la instrucción ustedes están enjuiciando públicamente y están

del servicio público de salud y del propio departamento ustedes con sus argumentos están dando crédito a una afirmación que ya

y es que cosas así sucedían desde el franquismo el cuestionamiento permanente parece evidenciar un claro objetivo

la fórmula que utilizan es cuestionar la honradez de sus profesionales

que estamos asumiendo responsabilidades públicas la fórmula es el todo vale es incomprensible

y que cuenta con un acreditado prestigio fuera de euskadi se vea sometido

por su parte a partir de los resultados en salud de euskadi la supervivencia del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares u otras les puedo asegurar

son profesionales de primer nivel ustedes pretenden hacer creer que muchas de estas personas han accedido a sus puestos de forma fraudulenta

lo niego taxativamente pero esto no significa que no se haya podido producir alguna irregularidad estos treinta y cinco años para esclarecer si esto ha ocurrido en la última ope trabajan los tribunales y si se ha

y se tomarán las medidas oportunas esto es precisamente lo que está ocurriendo en este momento y desde luego vamos a seguir colaborando para el esclarecimiento completo de estos hechos somos los primeros interesados el proceso judicial

la justicia está centrada en investigar cualquier posible irregularidad o responsabilidad en relación a cualquier actuación no sujeta a la norma en el curso de la ope bi mila hamasei bi mila hamazazpi

estamos colaborando con esta investigación con total transparencia y aportando toda la información

y se nos solicita en tiempo y forma

esa investigación interna se desarrolló con el máximo rigor y aplicando de forma estricta el procedimiento interno de osakidetza para estos casos

se investigó a miembros de los tribunales examinadores así como a personas aspirantes a las plazas todas estas entrevistas fueron grabadas

instructora de cada expediente en cada uno de los expedientes abiertos se redactaba un acta

persona instructora y persona entrevistada cada uno de los expedientes se cerraba con un informe de la persona instructora destaco a continuación un hecho muy relevante osakidetza envió por iniciativa propia

a las instancias que estaban comenzando a desarrollar la investigación judicial en ese momento

la información que se remitió a la fiscalía se inició por iniciativa propia motu proprio con la inequívoca intención de facilitar la investigación a partir de ese momento inicial

el juzgado ha solicitado complementar la información que en su día se envió a la fiscalía todas las solicitudes de información se han atendido en tiempo y forma incluidas las grabaciones a las que ustedes hacen referencia toda la información que se ha requerido

así lo hemos hecho así lo vamos a seguir haciendo insisto máxima colaboración y máximo interés en el esclarecimiento completo de los hechos también ustedes han tenido acceso a consultar toda la información disponible

es pleno el departamento de salud y osakidetza han hecho todo lo que ha estado en su mano para colaborar y culminar

y lo vamos a seguir haciendo osakidetzak hasieratik hartu ditu bere gain erantzukizuna eta konpromisoa

bere gain hartu du osakidetzak termino las y los profesionales de especialidades médicas

merecen todo el respeto se han preparado y han accedido a sus puestos por mérito y capacidad

de que esto no haya podido no ser así en algún caso aunque yo no tengo ni he tenido nunca constancia de ello

si así ha sido en esta última ope están los tribunales de justicia con los que colaboramos y seguiremos colaborando con transparencia la justicia está actuando solo pido preservar la presunción de inocencia de las personas

que sigue prestando cada día un servicio de primer nivel de calidad al conjunto de la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko

y otra dar trigo señora murga nik ez dakit zuek

aunque sea la sede parlamentaria mesedez

sinistuko dizut deme razones

admitamos que la investigación tuvo seriedad tuvo rigor y estuvo correctamente planteado entonces

a la justicia por qué fueron tan cobardes y a la vez tan prepotentes por qué por qué son tan cobardes y a la vez tan prepotentes

no sé si me comprende creo que no cuando décimos que ha perdido toda la credibilidad cómo quiere que la creamos por ejemplo visto lo visto cuando el portavoz del gobierno dice que ninguna documentación se ha destruido cuando todo lo que ha estado diciendo ya hemos comprobado que ha sido mentira

ustedes a todo el mundo nos piden datos datos pruebas eta hemen datuak frogak

señora murga yo no le he pedido una rendición de cuentas le he hecho una pregunta tiene intención de colaborar de una forma eficiente con la justicia en el llamado

porque hasta ahora no se ha visto ha optado por defenderse

mire señora consejera ya no le quedan ni más excusas ni más pretextos ni más comodines de la transparencia y de esas campañas de ataque al gobierno porque no es así y no se lo cree nadie solo nos han faltado las palomitas en este tiempo en el que cada paso que han dado era más torpe que el anterior han subestimado la participación ciudadana que yo ayer mencionaba a la hora de colaborar en los casos de corrupción

en contra de leyes como la de ayer pero no cuentan con que hay personas valientes que no se van a callar y que van a defender el bien común gracias a rober

y cada vez son más véanse las denuncias que se van incorporando al sumario

denuncia de la prueba de urología donde se describe cómo se pasaron los exámenes a los elegidos en casa del propio autor del examen el pucherazo de galdakao

el hecho de que el autor del examen de digestivo y hoy imputado

cirugía plástica la juez admitió a trámite una detallada denuncia que alude a delitos de prevaricación e infidelidad en la custodia del documento público

se les ha llenado la boca de transparencia y rigor en la investigación y escuchamos

se concluye que en angiología preocupaba más la filtración de las denuncias

y ni siquiera se recogieron actas de estas sospechas en cardiología se reprobó a un miembro del tribunal por hacer declaraciones a los medios de comunicación

hubo un intento de llevar a la fiscalía a los tres denunciantes por tentativa de actuación fraudulenta y con ese objetivo

al jefe de los tres anestesistas y la instructora ni siquiera sabía que era opositor en digestivo hubo que interrogar al autor del examen por segunda vez porque la instructora

instructora de cardiología expresó que desea que se resuelva internamente

es usted peruano sí y vive en perú no no no quiero decir que ahora vivo aquí pero su familia vive en perú sí

usted aquí es un inmigrante con galones pero quiero decir que ha venido a estudiar aquí y se ha quedado en este momento hablar de separación familiar recuerda a trump pero no es este el caso este es el rigor señora de la investigación que ha hecho osakidetza

interrogatorios y de los que han puesto como instructores a desarrollarlos entiendo la dificultad que usted tiene de aceptar las filtraciones y que estas sean vox populi pero ahora que sabemos que sabe

yo le pido voluntad le pido voluntad para cambiar el sistema corrupto

porque es obvio que quien tiene algo que ocultar nunca trabajará por esclarecer

tiene usted algo que ocultar señora murga sea valiente y no mire usted también a otro lado

y su credibilidad se agota mila esker eskerrik asko macazaga

señora ubera señora macazaga respecto a las preguntas directas no tengo nada que ocultar

nunca he tenido nada que ocultar ustedes prefieren seguir cuestionando y denostando el servicio público de salud

sí todo su argumento en este caso el que están dirigiendo hacia mí se apoya en algo que alguien dice que dije

cómo decírselo con más claridad yo no lo dije prueba de lo poco solido que son sus argumentos ahora se ponen esto por bandera

he defendido un servicio público de salud con igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales y esto lo sabe todo

siempre he defendido esta forma de acceso con igualdad de oportunidades en salud y en todo por supuesto en todo caso

a qué viene esto después de quince años por qué una persona que da tanta importancia a este tema conocía filtraciones ha esperado quince años

su intención para mí es evidente pero mi intención también lo es no estoy prejuzgando la existencia o no

para eso están los tribunales en los que confío plenamente

el departamento de salud y osakidetza estamos colaborando investigación tanto a iniciativa propia como todo en todo lo que nos solicitan mi objetivo como consejera es culminar esta ope con todas las garantías

esta es mi intención por la que me preguntan y un nuevo modelo de oferta pública de empleo

y los mejores profesionales no son palabras son hechos la información remitida

quiero insistir que fue una documentación inicial se envió a iniciativa propia nadie había pedido nada se remitió una información de la investigación interna para contribuir al esclarecimiento de los hechos según se iba

se hizo en aquel entonces hace casi un año

dieciocho de julio veintiséis de julio y veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho es indudable que toda esta información remitida ha servido de base para abrir una instrucción en el juzgado número dos de vitoria gasteiz es también indudable que cuando la jueza

se ha remitido siempre en tiempo y forma conocía la existencia como ustedes y todo lo que ha requerido se ha enviado una vez que la jueza

enviando como he dicho en varias veces nos solicitó ampliarla en dos ocasiones así lo hicimos la primera vez el día ocho de enero y la segunda el día

en ambos casos hemos actuado con rapidez absoluta trasparencia y enviando toda la información solicitada

vamos a seguir con hechos colaborando con la justicia

porque creemos en la justicia y queremos que se resuelva el proceso para culminar la ope y

de igualdad de oportunidades para aquellos que se han presentado no es justo

diario y el cuestionamiento al que ustedes están sometiendo a los procesos de selección y provisión en general y a cualquier actuación

en relación a los instructores de los informes internos que se realizaron y en concreto ustedes han señalado

esta persona es una funcionaria de la administración vasca esta instrucción la realizó ella y otras siete personas instructoras

realizaron el trabajo y lo hicieron en el ejercicio estricto de sus funciones y todo ese material

en la fiscalía no es justo un juicio público paralelo se valen para ello de todo porque para ustedes todo vale

tenemos nada que ocultar ante el proceso judicial que se ha iniciado las personas que trabajan en el servicio público de salud se sienten orgullosas de haber logrado realizar sus estudios en aquellos casos que ha sido así culminar su especialidad

por sus propios méritos y capacidades las y los responsables de las unidades y servicios y más importante los pacientes aprecian a sus profesionales por su trabajo y desempeño siendo los propios profesionales los primeros que están satisfechos por el trabajo bien hecho

lo es porque durante más de tres décadas ha contado con los mejores profesionales que han accedido realizando ope personas comprometidas con la sanidad pública y un servicio de calidad que desean seguir realizando reitero en esta cámara

de seguir colaborando con la justicia aportando todos los recursos a nuestro alcance y también insisto en mi compromiso de seguir trabajando

consejeros consejeras compañeros y compañeras

ser tan densos en las intervenciones en este parlamento me pregunta es sencilla señora consejera hace cuarenta años comenzó su andadura el módulo psicosocial de cruces el

que ha tratado en dos mil dieciocho a novecientos personas prácticamente habitantes del lutxana retuerto burceña han sido asistidos por el módulo

se les ha informado que se finaliza el concierto el convenio de financiación con dicho centro después de cuarenta años es esto cierto

uria jauna eguerdi on guztioi el módulo de asistencia psicosocial de cruces es una iniciativa social que merece todo el respeto y reconocimiento del departamento de salud sin embargo

que ha llegado a su fin y que es improrrogable al haber alcanzado el máximo legal de cinco años asimismo quisiera dejar claro que no se va a dejar de prestar el servicio a nadie sino que se va a ofrecer a partir de ahora con recursos propios de osakidetza de este modo

pasa a disponer de la oferta asistencial que se ofrece

con la consiguiente nueva ubicación y nueva organización del servicio no supone un retroceso sino una mejora en la atención a la salud mental

y un uso responsable y eficiente de los recursos públicos que es también nuestra responsabilidad gurutzetako

bakartxo tejeria andrea compañeros y compañeras

usted sabe señora consejera que no es posible lo que plantea hay varias preguntas que nos tenemos que hacer qué hace el modulo

lo hace osakidetza en barakaldo bueno son tres preguntas que tendríamos que ponernos de acuerdo qué hace el modulo

programa de atención infantojuvenil especialmente adolescentes con comportamientos antisociales

un programa de atención a mayores en riesgo en consulta y en domicilio un programa de acompañamiento terapéutico un programa de atención a grupos terapéuticos

programas de intervención psicofarmacológica y terapéutica en ludopatía

en barakaldo es necesario y en la margen izquierda es necesario luego comentamos algunos datos

de barakaldo o el servicio infantojuvenil de barakaldo es evidente que no pero no es una retórica que se me ocurre

es el abordaje psicosocial de los problemas de salud

o es la prioridad de grupos vulnerables como objeto de atención como las mujeres maltratadas los y las discapacitados los mayores y su soledad los inmigrantes

no lo quieran hacer no lo pueden hacer muchos profesionales muchos amigos y amigas estarían muy interesados en hacer este tipo de actividades no lo pueden hacer no conocemos ninguna auditoría del módulo en cuarenta años que ha hecho el departamento de salud no conocemos ninguna evaluación ni cuali ni cuantitativa de las actividades que hace qué

criterios burocráticos criterios administrativos de qué estamos hablando de ahorrar ciento cincuenta y tres mil euros

disminuir las políticas de inversión social en la margen izquierda de eso estamos hablando

la más castigada por la tasa de paro la más castigada por el número de parados de larga duración

de sesenta y cinco años veintitrés por ciento de los mayores de bizkaia y de la comunidad autónoma

quién ha tomado esta decisión qué despropósito es este por qué

que tienen cierto éxito novecientos personas de cobertura en un trozo de barakaldo todos en el ayuntamiento de barakaldo

en el dos mil trece todo el parlamento por unanimidad apoyo su continuidad

señor uria estamos hablando

una ilegalidad al pretender que se supere el máximo legal establecido para los contratos de gestión de servicio público adicionalmente a este hecho

pretenda convencernos de que la privatización

denominar es en este caso la mejor opción decía además usted en su pregunta que no consta en ninguna evaluación auditoria o valoración

conllevan un seguimiento y un control también en este caso

documentación memorias de actividad con los diversos programas ofrecidos recursos humanos presupuestos datos de actividad etcétera insisto el módulo de asistencia psicosocial de cruces

y reconocimiento no obstante osakidetza y el departamento de salud

de procurar siempre la mejor atención posible para todos los pacientes y con equidad la mejora debe ser y es nuestro objetivo también en este caso y la decisión adoptada responde a diversas razones bien fundamentadas

a una necesidad de cumplir la legalidad en el ámbito contractual como no puede ser de otra manera es coherente con nuestra apuesta por el sistema público

que quieren dar respuesta a estas necesidades para con una organización planificación y gestión de la estructura conseguir ir mejorando de forma importante la atención de la salud mental para esta población

consejero consejeras señorías buenos días de nuevo bien vamos a cambiar de plano

políticas culturales porque yo creo que es bueno que hablemos de documentos que

fueron concebidos pues para hacer un desarrollo de la cultura en este país que han tenido una andadura que es un buen momento para analizar a través de una interpelación al consejero de cultura y política lingüística

de cultura en la explicación de los planes del señor zupiria para la legislatura presente en materia cultural y ahí tuvo un especial protagonismo porque lo tiene que tener efectivamente

anteriores y kultura auzolanean

lo que se puso en marcha en la anterior legislatura y en palabras del consejero también en esa comparecencia era por donde había que continuar y es un buen momento entonces para este análisis y por eso mismo es una interpelación fundamentalmente con carácter informativo saber un poco cuáles son las características de la evolución de ese plan de cultura

que tiene el protagonismo que el propio gobierno vasco le dio en la anterior legislatura y le ha querido seguir dando en esta y tenemos que recodar lógicamente lo que es kultura auzolanean

fue un instrumento y a acordar entre agentes públicos y privados la visión estratégica los criterios de actuación las prioridades para el

seguir siéndolo el acuerdo el consenso la colaboración institucional entre los distintos sectores culturales como elementos

desarrollo para esa posición cultural

entendemos y podemos entender y es lo normal cómo desde las instituciones públicas

proyectos y de los elementos claves de la gestión en la comunidad autónoma vasca estaban ahí fueron muchas las personas

en definitiva ahí está y en ese sentido además de los antecedentes hubo ese trabajo que vimos a partir

que ha ido evolucionando durante el tiempo es un buen momento entonces ahora para saber dónde estamos y que nos puede aportar y que nos puede decir el departamento de

este proyecto kultura auzolanean bien atendiendo y viendo la información que el propio gobierno da a través de su

se califican como cerrados muchos hay otros abiertos hay otros por eso mismo hay que ver un poco por donde hemos discurrido se han tocado a lo largo de todos estos años cuestiones

de características muy distintas desde el propio funcionamiento

en su comparecencia inicial del observatorio vasco por la cultura como elemento

pasando por las fábricas de creación las políticas fiscales la oferta de modelos y vías de financiación otra serie de cuestiones muy concretas kulturklik

el cine en euskera el archivo de danza

cuestiones que tenían que ver con el libro con la creación de la oficina de la música con

con otra serie de cuestiones que por ejemplo alguna que también

no pudo ser se trajo al parlamento se tuvo que retirar lógicamente tiene que seguir un desarrollo porque esa ley está previsto que entre en este parlamento o sea

la red vasca de lectura pública red de museos lo que tenía que ver con la ley de patrimonio cultural hemos visto que tuvo y que ha tenido su materialización otras series de cuestiones

de las mujeres en la cultura mapa de espacios de creación apoyo a difusión de otros tipos de proyectos sobre la cultura vasca el euskera

han tenido que tener también un desarrollo una evaluación todos esos proyectos que se calificaban como abiertos de la misma manera que lo tendrán esos planes de fomento de la lectura o repensar la articulación sectorial

el mapa de cartografía de espacios de creación de la comunidad autónoma vasca las políticas

son elementos que ahí están como base y algunos que

o presentar el propio consejero en relación con lo que son sus proyectos el desarrollo de los mismos y las posibilidades

sobre todo en base a la experiencia y habrá más proyectos no cabe ninguna duda porque efectivamente

en la comparecencia de presentación de las líneas estratégicas de la legislatura que se está haciendo a través del programa kultura auzolanean lo que

aunque reconoció que y lo dijo en aquel momento que se está devaluando lo que ha supuesto ese plan

seguían convencidos de la necesidad de un plan que articule los espacios de colaboración coordinación corresponsabilidad de los agentes implicados pero la continuidad no es suficiente y reconoció que hay que afrontar algunos cambios y efectivamente pues algunos se habrán hecho por eso mismo yo creo que es un buen momento para hacerse en esos

cómo se ha ido materializado esta cuestión hablaba desde luego

en el plan kultura auzolanean el observatorio vasco de la cultura en el que

o por ejemplo el consejo vasco de la cultura donde había que se requería una reflexión en profundidad

para todo para intentar diseñar una valoración de la cultura es decir pues esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan por eso mismo

de esta cuestión en esta interpelación que nos diga que intenciones del gobierno vasco en relación con el desarrollo del plan kultura auzolanean para lo que queda de la presente legislatura

lo que puede ser o analizando también o el mismo valorando lo que puede ser el balance de cambios reflexiones continuidad de lo que hablaba en su exposición en relación con los proyectos con las realidades culturales de este país

yo creo que hay que ver hay veces que no se habla tanto del continente

lo oímos tanto en la actualidad pero entendemos que tendrá contenido y tendrá un desarrollo

legebiltzarkideok barrio jauna efectivamente señor barrio tanto en nuestra primera comparecencia ante la comisión de cultura de este parlamento al inicio de la legislatura

en comparecencias posteriores me he referido al plan kultura auzolanean cultura en común como el marco de trabajo y colaboración en el que nos proponíamos defender aspectos relevantes de las políticas públicas vascas

kultura auzolanean es en primer lugar un modelo de relación con otras instituciones públicas y agentes

y es también un programa de trabajo acordado que prioriza proyectos y establece tareas en un marco de colaboración

en reforzar un modelo de gobernanza que concede

tanto con las otras instituciones públicas de nuestra comunidad también competentes en materia de cultura como con los representantes

kultura auzolanean es por tanto la reivindicación del trabajo en común o de una gobernanza compartida

hakoba el primer compromiso tenía que ver con la puesta en marcha de un foro interinstitucional que reuniera a representantes del departamento de cultura del gobierno

de los ayuntamientos de las tres capitales y de eudel de acuerdo con ese compromiso hemos configurado un foro al que denominamos hakoba foro de coordinación de las administraciones públicas en materia de cultura y lo hemos hecho siguiendo el modelo que ya existía en materia de política lingüística

este foro informal nos ha permitido a los representantes de las diferentes administraciones públicas vascas analizar propuestas e iniciativas en materia cultural

kulturaren euskal kontseilua hakoba no viene a sustituir a ningún otro foro

para que las diferentes instituciones coordinemos nuestras políticas públicas en materia de cultura segundo compromiso consejo vasco de la cultura en cualquier caso la puesta en marcha de hakoba no resta

que se mantiene como el foro principal en el que las administraciones públicas presentamos y debatimos con los representantes del ámbito cultural en él presentamos nuestras políticas en él informamos de nuestra actividad y allí acordamos las iniciativas pertinentes

de representación pensado para la toma de decisiones ni para la gestión cultural no ha entrado en colisión con ninguna otra institución y le concedemos un valor primordial como espacio de reflexión como espacio de presentación de propuestas

y de alcanzar y definir consensos tercer punto la representación sectorial en este consejo vasco de la cultura

como es el de abrir un debate sobre la representación o la interlocución con las diferentes asociaciones sectoriales con el objetivo de agilizar la relación con ellos

lo hemos planteado porque consideramos que la situación actual en nuestra opinión adolece de una excesiva fragmentación de una visión demasiado sectorial en un momento

este planteamiento lo hemos llevado a las reuniones del consejo vasco de la cultura y lo hemos planteado también en la relación bilateral que mantenemos con las diferentes asociaciones que tenemos identificadas en nuestro mundo de la cultura no es un tema sencillo pero creo que todos compartimos que es necesaria una reflexión

es propia de cada sector y estamos en ello cuarto punto observatorio vasco de la cultura el cuarto eje que planteamos como eje tractor del programa kultura auzolanean es la actividad del observatorio vasco de la cultura kulturaren euskal behatokia

tanto behatokia creado en dos mil cuatro como propuesta del plan vasco de la cultura como

se han convertido en una herramienta imprescindible para el conocimiento y seguimiento de la actividad cultural

así como una base para la realización de planes estratégicos sectoriales y estudios de situación para esta legislatura se han concretado los dos

en primer lugar conscientes de que el observatorio adscrito a la dirección de promoción de la cultura

su ámbito de análisis a las actividades de creación promoción y consumo cultural propusimos ampliar su actividad también a las políticas de patrimonio en segundo lugar planteamos que el observatorio ampliara su ámbito de análisis

y sumara al análisis de las políticas culturales y el patrimonio

y yo con brevedad porque yo creo que nos ha informado de lo que queríamos de plantearse ese desarrollo de a partir planteamiento inicial de los objetivos de la legislatura y efectivamente

de algunos cambios y hablaba de que la continuidad tenía que estar alternada con esos cambios y esas nuevas

de las que usted nos acaba de decir en las posibilidades de trabajo posterior y efectivamente

con esa representación sectorial o con algunos análisis del trabajo y

la fragmentación del sector etcétera pues son elementos que yo creo que merecen esta reflexión primera que nosotros le pedimos y le agradecemos pero también un documento yo creo que

a veces los documentos hacen que se reordenen las cuestiones

yo creo que traeremos con el fin de consensuar con los grupos parlamentarios

poder hablar de traer una especie de balance o de memoria pero a la vez esa definición

de los objetivos de los proyectos de los pasos de los proyectos que se están realizando es decir esa segunda fase de kultura auzolanean de la que usted nos hablaba porque en esos pasos concretos a los que usted se refería de ese fondo permanente de coordinación de la segunda época de cultura usted mismo ha dicho

en el propio gobierno yo creo que es bueno también y aparte de todo lo que tiene que ver con las relaciones

complicadas con el sector yo creo que sí que es bueno de la misma manera que tuvimos en su primera fase un documento sencillo pero claro en relación

que se iban a abordar a través de los años yo también creo que es bueno que reeditemos que retomemos de alguna manera la posibilidad de tener un documento vivo

esa reflexión sobre la representación sectorial y su fragmentación y cómo se tienen que retomar esos cauces de comunicación y de participación yo creo que sí que es cierto

de seguimiento del plan auzolanean en lo que usted ha referido como esta segunda época es algo que necesitamos porque tenemos que saber también cuáles son los proyectos en cartera

y la política cultural ligada precisamente al contacto que se tiene tanto el institucional con otros representantes de las políticas de cultura como del sectorial

pero tan importante también yo creo que es bueno que podamos disponer

por ejemplo habré dicho en dos mil diecinueve pues tenemos cuatro o cinco proyectos

tener ese documento a partir de ahí porque será bueno también que en esta legislatura

en su segunda fase el plan kultura auzolanean para luego poder tener

cómo se va a relanzar hacia el futuro que yo creo que es lo que se necesita así que con ánimo constructivo señor consejero y a partir de esta cuestión nosotros pediremos al gobierno no sé qué le parecerá a usted pero que concrete o que valore en un documento

de cultura y política lingüística esta segunda fase del plan kultura auzolanean con
las características de las que le halo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea señor barrio yo creo que no tendríamos ninguna dificultad elaborar una especie de relación o guion de diferentes documentos que se han elaborado hasta el momento y de otros que se puedan producir en los próximos meses hasta el final de la legislatura también creo que no sería bueno

que elaborara documentos que tiene que ser fruto de un acuerdo y de un consenso con los representantes

en el consejo vasco de la cultura nosotros por nuestra parte como departamento en lo que afecta a la acción gubernamental tenemos el compromiso de presentar

un plan estratégico denominado kultura

dos mil diecinueve dos mil veintidós en el que se establecen las líneas estratégicas

desarrollar e impulsar en los diferentes ámbitos de nuestra competencia ese sí nos corresponde a nosotros los otros documentos que podríamos incorporar a esa lista algunos de ellos tiene que ver con la actividad ordinaria o extraordinaria del observatorio vasco de la cultura

de acuerdo con las peticiones que recibe desde el propio consejo vasco de la cultura y hay otros documentos que deberían ser fruto del trabajo que

con los diferentes representantes del sector cultural en el seno del consejo vasco de la cultura por ejemplo usted ha hecho referencia

reordenar la representación sectorial no se trata simplemente

interlocuciones se trata también de en colaboración con ellos definir cuáles son los proyectos estratégicos sobre los que debe trabajar

le puedo subrayar por ejemplo ámbito de las artes escénicas se considera que la representación sectorial que existe en estos momentos puede ser la adecuada y el siguiente paso

en la elaboración de una propuestas de trabajo por parte de los propios representantes de los sectores en colaboración con las administraciones en el ámbito de la formación

de la comunicación de la innovación en el ámbito de su presencia internacional y en el ámbito de la visibilidad del sector cada uno de esos

está más o menos definido y debería dar como producto un proyecto de elaboración y de desarrollo podríamos decir otro tanto del ámbito editorial que plantea su

la visibilidad y el impulso a los mercados interiores a las ferias interiores o del musika bulegoa que fue un fruto de la reflexión que se realizó

está a punto de culminar en un proyecto de fusión como una única organización quiero decirle que podemos realizar si le parece interesante

de esta reflexión de estos años pero creo que sería importante también contar con los propios representantes sectoriales en el consejo vasco de la cultura existen cinco representantes nombrados a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios de este parlamento tienen ustedes también ahí una forma de encontrar

de la cultura y bueno quedo a la espera de su propuesta de moción y de que podamos acordar e incorporar a la misma
las relaciones de proyectos y trabajos que nos parezcan a todos interesantes eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera

ha habido polémica primero porque el gobierno prefirió no atender a los informes técnicos que ya alertaban de que la contratación a través de un convenio presentaba deficiencias e incumplimientos legales segundo

al enterarse de que se solicitaba voluntariado especializado sin ningún tipo de remuneración económica por su trabajo el resultado

por parte de quien gobierna en las instituciones públicas ha tenido consecuencias graves para la ciudad y su imagen turística

de completo y ha provocado que la mayor parte de las personas visitantes

con una asistencia muy por debajo de la esperada lo que ha repercutido muy negativamente

solo se puede tildar de fracaso por la mala gestión y programación del evento

para vitoria gasteiz si se gestionan de una manera adecuada y si retornan en la ciudadanía y la economía local

que se gestiona únicamente para beneficio de unos pocos mientras las necesidades básicas de la gente siguen sin ser cubiertas el gobierno vasco es corresponsable

un dinero público inadmisible dada la mala organización y gestión turística del evento ante esta situación

para que el dinero público que se invierta desde el gobierno vasco cumpla con los objetivos de promoción de la cultura y el deporte

en nombre de todo el equipo euroliga quiero agradeceros y felicitaros por vuestra colaboración para que esta final four haya sido un verdadero éxito

y a su vez en el país vasco ya que los miles de seguidores de los equipos participantes han podido disfrutar de un fin de semana cargado de actividades relacionadas con el baloncesto

estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el evento y por el apoyo y promoción que ha recibido desde las más altas instituciones un abrazo

veintinueve de mayo de dos mil diecinueve diez días después de finalizada la misma

tenido varias oportunidades de expresar cuáles eran los objetivos que el gobierno

el primer objetivo era convertir a gasteiz en capital europea del baloncesto el segundo asumir la responsabilidad de organizar con solvencia un acontecimiento

cuarto nos proponíamos ofrecer a cuantos nos visitaran la posibilidad de conocer nuestro país y asegurarles que iban a poder disfrutar de una experiencia satisfactoria y por último nos pusimos como objetivo aprovechar la celebración de la final four para proyectar al mundo

acogedor y preparado para acoger y organizar todo tipo de eventos

ha sido la primera vez que un evento de esta magnitud ha llegado a una ciudad de la dimensión de vitoria una ocupación del buesa del noventa y ocho por ciento

un esfuerzo de planificación y organización solvente el mayor dispositivo de seguridad organizados a la fecha en euskadi eficacia y fluidez en los transportes entre la ciudad y el buesa y entre bilbao donostia y gasteiz

un alto nivel de ocupación de los hoteles de donostia y bilbao

de pasajeros con respecto a años anteriores quinientos cincuenta periodistas acreditados

y un alto número de publicaciones y anuncios en todos los estadios de baloncesto de europa donde se ha disputado la euroliga que han hecho posible una proyección internacional sostenida de gasteiz y de euskadi de acuerdo a estas magnitudes

ha sido alto y la euroliga es de la misma opinión eskerrik asko

para empezar señor zupiria debería usted de reconocer

no ha cumplido las expectativas a pesar de los esfuerzos del señor urtaran en campaña de vendérnoslo como el evento más importante de la historia de gasteiz tengo que reconocer que como narrador enumerando y leyendo no tiene usted parangón pero es que hablábamos de asumir responsabilidades porque el evento más importante según ustedes de gasteiz

de los cinco millónes de euros que ha costado cuatro de ellos salen de las arcas públicas

sin contar otros gastos como las medidas de seguridad o la contratación

la promoción del deporte de élite y la proyección exterior el impulso del tejido cultural local

para toda la ciudadanía vasca porque en este acto han brillado por su ausencia el pnv ha utilizado este evento como un argumento electoral en campaña ha sacado pecho de ser el partido que ha traído el evento soñado

sin embargo a pesar de que lo anunciaron como un éxito el pabellón no se ha llenado y lo que es peor los precios de algunos hoteles y apartamentos han sido abusivos lo que ha provocado que no se llenen las plazas hoteleras el ambiente en la calle tampoco ha sido el esperado y parte de la hostelería se siente engañada porque no han tenido la afluencia esperada

a entradas y estaba todo adjudicado muchos aficionados locales no consiguieron un pase cuando luego había huecos ahí está la clave

de inversión pública que salen del bolsillo de todas para que repercuta cero en la ciudadanía y en los comercios y en las empresas gasteiztarras y en la promoción de la cultura y el deporte menos todavía

de su celebración cuando se quiso sostener el acto con voluntarias fomentando un modelo de precariedad que parece que es el modus operandi de los proyectos financiados por su departamento la ciudadanía

que puede suponer un evento internacional de este calibre ha sufrido la privatización de espacios públicos parkings y cortes de tráfico para que los vips circulasen con comodidad en sus

y a la espera de los informes que ya hemos solicitado de impacto y eficiencia dígame cuál ha sido el retorno en materia de impulso de la cultura local y el fomento del deporte que nos ha dejado la celebración de la final four y no para el señor bertomeu sino para la ciudadanía de gasteiz

los objetivos que públicamente nos pusimos y a continuación le he indicado una serie de datos con los que se puede medir o no el grado de cumplimiento de esos objetivos yo creo que hay un debate que es perfectamente legítimo

con el grado de cumplimiento de los objetivos que también podríamos llevarlo a ese terreno el ámbito legítimo y de discrepancia es qué tipo de eventos queremos para nuestro país y nosotros además de los muchos que se desarrollan en el país también apostamos por la atracción de grandes eventos de carácter internacional además tenemos un mandato de este parlamento para que sigamos haciéndolo y así lo vamos a hacer eskerrik asko

señora etxebarrieta voy a tratar de sintetizar el proceso que hemos seguido para dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas por este parlamento en relación con la situación de las personas trabajadoras del hogar siempre ha sido una preocupación de primer orden para el departamento siendo conscientes de las dificultades que el asunto tenía dada la especial realidad del sector

no se debe a la falta de interés en ningún caso voy a comenzar dando cuenta de la guía básica de prevención de riesgos laborales para personas trabajadoras del hogar la cual ya como ha comentado usted fue remitida el pasado día once y esta guía es el producto de la revisión y adaptación de otra anterior que fue nutrida por las aportaciones

y hoy podemos afirmar que tenemos una guía amplia y completa un primer borrador se remitió a las cuatro centrales más representativas de euskadi y a cinco asociaciones que agrupan a personas trabajadoras del hogar

una colaboración que ha redundado en aportar valor añadido a la guía otro documento que hemos enviado el mismo día once a esta cámara es el informe jurídico sobre los efectos que tendría la suspensión de los artículos catorce punto tres del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez

habrá podido constatar señoría el informe es positivo respecto a la posibilidad del acceso a tales ayudas de las personas trabajadoras del hogar que se encuentren en situaciones de reducción de jornada o de excedencia bien para el cuidado de hijos o hijas o bien para el cuidado de familiares en situación de dependencia o de extrema gravedad sanitaria en esta caso la demora se ha debido

y respecto a este tercer documento del cual puedo entregar una copia si lo desea aunque solo en castellano ya que se está traduciendo

que entrañaba encargamos al departamento de sociología y trabajo social de la universidad del país vasco la realización del mismo a pesar de la experiencia del departamento universitario se han constatado las mismas dificultades que tendrá oportunidad de

la falta de datos homologados y ausencia de estudios concretos que estamos ante una realidad iceberg es decir una parte de la realidad del empleo del hogar se encuentra sumergida y su aproximación no es sencilla y las características de este sector de empleo al menos un treinta por ciento de las personas de trabajadoras del hogar en españa no se encuentran afiliadas en la seguridad social

del estudio sobre cualquier otra cuestión y aunque con reconocida demora vamos a cumplir con las iniciativas aprobadas por ustedes eskerrik asko

pues mire le voy a decir

no había preparado nada porque esperaba las respuestas que me iba a dar he leído y he tenido ocasión de leer el informe jurídico

demasiado tarde pero la célebre frase de nunca es tarde si la dicha es buena si he creído entenderle bien

había entreleído yo entre líneas pero no lo dice claramente es que no hay ningún problema para que las trabajadoras del hogar puedan acceder a este tipo de ayudas me alegra muchísimo que hayan llegado a este tipo de análisis bueno como muchas veces nos dice bienvenidas llevamos ya diciéndolo un rato pero nos alegramos de verdad

discriminación que no tenía ningún tipo de fundamento jurídico como lo dice el propio

con el tema de la guía hemos hecho una ligera comparación entre la primera que nos mandó esta segunda que nos ha mandado

y organizaciones que habían traído sus aportes hemos visto que algunos han sido incluidos otros no sí que querríamos saber cómo pretende socializar ahora esta guía había

sobre lectura fácil traducirlo a diferentes idiomas si van a tener en cuenta este tipo de propuestas que se les hacían no me voy a meter ahora con

con lo que comenta la guía porque no tenemos tiempo pero bueno sí que tendremos ocasión

considera de debatir en torno a esto porque sí que hemos visto que algunas cosas no han cambiado mucho y con el tema del diagnóstico también leímos que estaba traduciéndose

encantada cogeré ese trabajo ha dicho que está dispuesta a darme yo también le he traído otros trabajos con su permiso que me parece que se han hecho estos últimos años que son muy interesantes sobre el tema de trabajadoras del hogar

la situación de las mujeres en vitoria gasteiz y luego uno mucho más amplio que ha hecho mundubat sobre trabajadoras no domesticadas tiene mucha

muchos trabajos que retomar a partir de verano con el diagnóstico que ustedes han hecho con los diagnósticos que vienen haciendo las trabajadoras del hogar vamos tarde tres años vayamos a agarrar esos puntos que tenemos para trabajar por lo menos por nuestra parte seguiremos aunque sea siempre como último punto del orden del día pero no por eso menos importante trabajando el tema de las trabajadoras del hogar mila esker

efectivamente señora etxebarrieta queda todavía mucho trabajo

nos queda la labor de coordinar con el resto de departamentos implicados las acciones para mejorar la situación del sector de personas trabajadoras del hogar

medidas para hacer visible ante la sociedad el sector y concienciar sobre su importancia además de informar a las personas trabajadoras del hogar sobre sus derechos y obligaciones

una vez finalizados los estudios y la guía básica de prevención de riesgos laborales

que será tratado con el resto de departamentos del gobierno vasco que tengan alguna acción

acción y una vez aprobado por el gobierno lo remitiremos al parlamento por supuesto que la puesta en marcha de este plan

en las que estén agrupadas o representadas quiero finalizar reiterando mi compromiso con el sector

que vamos a realizar está nuestra intención de celebrar unas jornadas sobre la problemática del colectivo a las que estarán